itunaren akordioaren inguruko gakoak por eso consejero le preguntamos si podría explicarnos cuáles son las claves del acuerdo en relación al cupo que han adoptado aldez aurretik

histórico en euskadi el miércoles creo que fue un gran día para euskadi

desde el año dos mil siete no se reunía la comisión mixta del concierto para fijar los cupos euskadi eta espainiako

emateko gai izan gara hemos sido capaces de terminar

entre el gobierno español y el gobierno de euskadi hemos empezado a andar por la senda de la normalidad institucional ello tiene un valor financiero sí pero también tiene un valor

y esto es lo que quiero fundamentalmente poner en valor la existencia misma del acuerdo y la vuelta a la bilateralidad de ambos ejecutivos

que entró en vigor el año dos mil once si en aquel momento estuviera aplicado la ley

que obligaba a reestimar las cuantías del cupo revisando el cupo del año base y los índices de actualización hoy no estaríamos hablando de ninguna diferencia

ha sido posible hacerlo ahora por lo tanto no se ha hecho sino aplicar la normativa de la ley de cupo a las cifras recogidas en los presupuestos generales del estado para evaluar las diferencias se ha realizado conforme a la legalidad aplicable a los números del presupuesto y desde el conocimiento

gobiernos legalidad transparencia y conocimiento son los únicos ingredientes que se han utilizado para alcanzar este acuerdo además de la voluntad política de las partes

el éxito de este acuerdo es haber llegado al mismo no se trata de buscar ni vencedores ni vencidos como ustedes saben he solicitado la comparecencia del próximo miércoles para dar cuenta de todos los detalles a los grupos

no olvidemos que este es un acuerdo de gobiernos era nuestra responsabilidad por lo tanto es un acuerdo justo y coherente con lo establecido en el concierto económico

utilizando estrictamente el espíritu de la bilateralidad que en él se incluye el acuerdo suscrito contiene once puntos que explicaré como decía con detalle el próximo martes ahora tan solo dos cifras

de las discrepancias del periodo dos mil siete dos mil dieciséis en materia de cupo y políticas activas

que será el cupo provisional para el año dos mil diecisiete y que servirá

ley quinquenal konpentsatu beharreko zenbatekoak mila laurehun milioi eurotara heltzen dira para finalizar me gustaría volver a hacer hincapié

que supone entrar en un periodo de estabilidad y certidumbre en las relaciones financieras con el estado como les decía un gran momento para euskadi

bere tratamendu medikuarekin jarraitzeko laguntzak eskaini dituen lehenengo autonomia erkidegoa en el gobierno vasco hemos mostrado en todo momento rechazo al real decreto dieciséis barra dos mil doce

hemos tomado medidas eficaces para paliar sus efectos así en dos mil trece se aprobó el decreto que ha permitido otorgar ayudas

sus tratamientos médicos y paliar el incremento del copago farmacéutico además el gobierno vasco mantiene un recurso

ante el tribunal constitucional por tanto nuestro criterio es claro compartimos lo establecido en la enmienda transaccional aprobada

con responsabilidad y coherencia con las ayudas previamente establecidas pero permítame señora blanco recordar

al gobierno vasco en octubre del dos mil trece se aprobó una enmienda transaccional entre el partido socialista de euskadi y el partido nacionalista vasco una enmienda que instaba al gobierno a adoptar medidas para garantizar a las personas en situación de necesidad y enfermedad

y sin embargo señora blanco ustedes eh bildu en aquel momento se abstuvo

el gobierno vasco ha sido impulsor y pionero en este sentido cabe recordar que euskadi ha sido la primera comunidad autónoma en tomar medidas que se llevan aplicando por cuarto año consecutivo de forma eficaz en este tiempo

de los más de veinte coma cinco millónes de euros destinados por el gobierno vasco a estas ayudas eta orain legebiltzar honetan

dugun lo están compartiendo lo están analizando pero ni un paso

en el caso de las personas desempleadas solo atiende a las que están no en el suelo en el subsuelo

euros por cierto el real decreto del señor rajoy en este punto es incluso más permisivo porque a las personas que cobran una prestación social están exentas del medicamentazo

los dos grupos que sustentan al gobierno incluido es que atienda a más personas que ayude también a otros colectivos que compense a todas las personas que están en situación de desempleo y las que cobran

unas cincuenta mil personas más según nuestros cálculos y sí nos abstuvimos

cuatro años incluir el punto que se recoge en esa enmienda transaccional

ez y mire que lo hemos intentado enmienda a los presupuestos eh bildu para ampliar la partida del copago farmacéutico los de los presupuestos sociales votaron en contra tampoco han ampliado la partida que es ampliarlo lo podrían haber hecho ustedes pero no lo han hecho ni han modificado el decreto como le he dicho

toda y más y más no por capricho para atender a gente que ahora mismo no se está atendiendo por lo tanto cumplan

porque puede ser le puede parecer que el gasto que tengan que hacer algunas personas en medicamentos sea poco a cuánto puede corresponder señor darpón a seis a doce a dieciséis barras de pan a cuántas

no olvide que hoy en día hay muchas familias que también tienen que contener el gasto incluso

no llegan a fin de mes como dije hace dos meses cúmplanlo porque es un buen acuerdo y es necesario eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea darpón jauna zurea da hitza

señora blanco mire ustedes se abstuvieron

cuatro años cobrando fundamentalmente gracias

a los grupos que hoy apoyan al gobierno cambie usted el discurso

al gasto que a la necesidad porque muchas veces la necesidad está cubierta

cuatro años ayudando a las familias con el gasto pese a su abstención y como le he dicho estamos trabajando para dar cumplimiento

enmienda que no es suya es conjunta señora blanco no se le olvide y es fácil de comprender que

dos meses para modificar un decreto que lleva su tiempo

administrativo y como le he dicho estamos analizando las posibilidades y su implicación presupuestaria así como el mejor modo de llevarla a cabo como usted conoce

y ya se aplicaba en euskadi la exención por lo tanto señora blanco no se apunte lo que no le corresponde esté usted tranquila esas familias que esperan seguramente

azpiazu sailburua trabajadores de la estiba también en el año dos mil quince

millónes de euros por manipular el sistema eléctrico en el año dos mil trece

de frio y uno de los puntos álgidos de la crisis con el único fin de ganar más dinero a costa del bolsillo de todos también del gobierno vasco

anticorrupción denunció esas prácticas ante la audiencia nacional también en el día de ayer iberdrola bajo parece ser órdenes del gobierno entró con una legión de antidisturbios a cortar

volviendo al contexto de las investigaciones a iberdrola el consejero respondía a preguntas de los medios por una parte es cierto afirmaba que no realizaría especulaciones pero por otra parte también

de una forma transparente y atendiendo a las reglas del juego por tanto le pregunto señor consejero piensa usted que iberdrola es una empresa transparente

hace referencia a aspectos que se nos escapan a nosotros en estos momentos se encuentra en vía judicial como usted ha dicho por tanto máximo respeto a ese sentido pero si nos centramos

no le voy a dar ni creencias como dice cree usted ni opiniones del gobierno me voy a ceñir a algunos datos publicados en ese sentido en referencia a la transparencia

voy a hacer referencia a un informe de transparencia de responsabilidad fiscal por poner un ejemplo que hace referencia a todas las empresas del ibex treinta y cinco como usted sabe se someten a principios y directrices estrictas de actuación que son examinadas analizadas y recogidas en informes

la transparencia en materia fiscal bueno es bastante estricta y a las mismas empresas les compete

y dar los datos correspondientes entre el dos mil catorce y el dos mil dieciséis ha mejorado ostensiblemente y además existen canales de comunicación canales de denuncia como herramienta útil para mejorar esa transparencia

ránquines relativos a aspectos como cumplimiento de normativa tributaria código de buenas prácticas tributarias facilitar información de sus activos y además se sitúa entre las empresas que mejor detallan y hacen visible la información de todas sus auditorías eso solo en lo que hace referencia a materia fiscal en definitiva

más que adecuadamente los requisitos exigidos y va un poco más allá por tanto es un valor que desde el gobierno exigimos a todas nuestras empresas y en este sentido

señora consejera si hablamos de transparencia en iberdrola y si hablamos de transparencia

conoce perfectamente este dato y está bien como se hace de lo que pagamos a iberdrola y a otras empresas en concepto de las ayudas de emergencia social para pagar las facturas que nuestros ciudadanos y ciudadanas no pueden hacerle frente estas investigaciones lo que están haciendo es demostrar

cuántas de esas facturas cuánto dinero hemos pagado de más a iberdrola en este caso por esas prácticas abusivas y yo creo que es en lo que tenemos que centrar

la pregunta también de transparencia porque evidentemente que cumplirán con muchas de las

requisitos que el ibex treinta y cinco ponga para las políticas de transparencia para sus propias empresas pero

prácticas que no parecen al menos transparentes y traíamos esta iniciativa además porque vamos a seguir trabajando en este tema porque queremos

de derechos porque no hay una garantía efectiva de que se esté cumpliendo la ley

empresas y de control también de estas prácticas pero también de control que nos parece necesario de los pagos que hace el gobierno tan de moda en los últimos tiempos porque tenemos que hacer el control de que esas ayudas de emergencia social que se están las empresas no estén haciendo prácticas abusivas con eso que nos están cobrando porque son empresas que juegan en función de la energía que enchufan a la red

pagan menos porcentualmente que las rentas del trabajo

en estos temas concretos de iberdrola de hacer trampas y de cometer presuntamente

del gobierno que se quedase primero con esa primera parte de la prudencia

la trasparencia a la hora de hacer los pagos por parte del gobierno y también una voluntad política clara perdón de recuperar esos pagos

entiendo señor martínez que quiera usted aquí mezclar muchas cosas aprovechando

sin embargo no mezclemos conceptos primero y principal

trabajar la comunicación interna y externa y todas nuestras ayudas y nuestras colaboraciones en la mejora de la gestión en una gestión avanzada como usted bien conoce todas están dirigidas a eso a mejorar la transparencia y la comunicación por tanto la postura del gobierno es clara en segundo lugar tarifario eléctrico evidentemente no es competencia de este parlamento ya nos gustaría que fuera pero no lo es es competencia del estado entonces le ánimo a que allí

sea allí donde la trabajen usted habla que de alguna forma no se cree lo de los índices de transparencia fiscal porque se hace ingeniería fiscal

el informe está avalado en datos luego vamos a ceñirnos a datos a datos que están medidos de acuerdo con unos índices y unas formas de medir

avaladas le gustaran a usted o no pero internacionalmente avaladas y son datos y como usted decía

abusivas todavía estamos en investigación que yo sepa todavía no se ha demostrado nada y las dos únicas sentencias que hay son favorables a iberdrola es decir se ha demostrado que no había nada por tanto vamos a ser prudentes como usted decía y vamos a esperar lo que da de sí esa investigación hasta el momento no ha dado nada de nada eskerrik asko

toca hablar de consumo y

no hay nada que mal esté que no sea susceptible de empeoramiento que tiene tres leyes

savignano y otra la de beryl la de sineto dice que si usted adquiere un producto y garantía de sesenta días ese producto está preparado para que se autodestruya el día sesenta y uno

ahí en la ley de savignano que establece que si usted

y no hace la reclamación oportuna no le llegará y que si la hace le llegará antes de que la reclamación llegue al destino y la beryl dice que

a la semana siguiente vendrá publicado en la revista del consumidor y que

de inaceptable y que justamente aquel que estuvo a punto de coger pero que lo dejó es el que se considerará como el mejor

sirve para hacer una caricatura de la realidad pero la realidad existe en el año dos mil dieciséis se tramitaron en euskadi por distintas vías

fundamentalmente reclamaciones que van en el campo de la energía en el campo de las telecomunicaciones también en los equipos informáticos en los electrodomésticos es decir que diecinueve mil reclamaciones son muchas y son

que puede tener dos caminos el camino judicial o el camino extrajudicial el judicial todo el mundo sabe que es

a veces casi sin salida sobre todo en el tiempo y el extrajudicial es el más pragmático el más eficaz

socialista dijo aquello de que los derechos de las personas valen lo que valen sus garantías y efectivamente para que uno tenga garantías sobre sus derechos necesita que estos sean agiles sean gratuitos que sean vinculantes en la resolución y en ese sentido desde hace ya mucho tiempo

sobre el consumo sobre los servicios que se consumen sobre los productos que se consumen en ese sentido su departamento ha hecho

durante tres meses está a punto de finalizar empezó en marzo terminará en mayo y en esa campaña pretende que sean más las empresas que se adhieran a ese sistema de arbitraje para que primero mediante una mediación y después mediante ese arbitraje vinculante

en un plazo muy prudencial aproximadamente en el plazo de tres meses desde que se plantean estas reclamaciones

adheridas se adhieran y que más consumidores puedan acceder a ellas en realidad estamos hablando de una fórmula que genera garantías de defensa a los derechos de los consumidores pero también genera confianza sobre los productos y servicios que dan

estamos hablando de un problema que nos afecta a todos los ciudadanos tarde o temprano y es interesante saber en qué momento está esa campaña qué resultados tiene
qué nos puede ofrecer al respecto como impulso de arbitraje de consumo muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

se acumulan cada año en el ámbito del consumo un buen número de reclamaciones no sé si por las tres leyes que ha enunciado

dos agentes dos actores interactúan en el mercado pero efectivamente coincido con usted en la necesidad de no solamente dar

efectiva en esa búsqueda de efectividad en la respuesta

mi departamento apuesta por la mediación y dentro de la mediación por la herramienta

que es una herramienta clave no solamente para defender los derechos de los consumidores no solamente para efectivamente generar confianza

sino que además es un elemento que puede ayudar a potenciar la cultura de consumo responsable ético y solidario por la que apostamos en esa búsqueda de promocionar

que como ha dicho es una vía extrajudicial que ahorra tiempo que ahorra costo que es más sencillo

que es voluntario se aplica cuando las dos partes están de acuerdo y que es vinculante ejecutivo y además gratuito efectivamente estamos desarrollando una campaña para promocionar la adhesión de más empresas de las que ya están en nuestro registro al sistema

esa campaña básicamente se apoya en la labor

especializado y formado para ese fin que hace que primero contacta con las empresas y después hace presentaciones individuales en las que se explica a las empresas

en esa campaña nos fijábamos al principio de la campaña que efectivamente empezó en marzo y acaba a finales de este mes nos fijábamos como objetivo que se adhiriesen novecientos empresas más cuatrocientos de ellas referidas a sectores sensibles del ámbito del consumo que generan un mayor número de reclamaciones a estas alturas puedo decir con los datos de que ya dispongo de que ambos objetivos ya se han superado en total son ya

nuevas empresas adheridas y esperando que ese número se incremente de aquí

de la campaña seguiremos con este tipo de campañas y además

ayuden a promocionar el sistema arbitral dijimos ya aquí en comparecencia en la primera comparecencia parlamentaria que afrontábamos las tres áreas de responsabilidad del departamento desde una visión transversal pues bien y en relación a esta cuestión

el criterio de la adhesión al sistema arbitral de consumo como

baremo positivo para la obtención de dichas

además de eso también debemos reconocer la importancia que tiene que los usuarios demanden este servicio que demanden la adhesión de las empresas al sistema arbitral de consumo

tanto en medios de comunicación como en redes internet etcétera a incidir sobre esta cuestión si consumidores y usuarios valoramos a la hora de tomar una decisión de compra este sistema esto hará que más empresas se adhieran al sistema
y por lo tanto potenciemos esta vía eficaz eskerrik asko sailburu jauna

señor lehendakari consejeros señorías últimamente y al abrigo del análisis que se está haciendo de los resultados de la reforma fiscal que pudimos acordar y que pactamos juntos hace poco tiempo hace tres años se han producido un cruce de declaraciones contradictorias entre miembros del partido que sostiene al gobierno

de incrementar la presión fiscal exprimir un poco más a las empresas para aumentar la recaudación y las diputaciones forales los diputados generales de los territorios que son todos de su partido parecen reacios a esa posición y dicen que solo quieren hacer pequeños retoques

en euskadi corresponde que usted fije esa posición descarte esos debates que generan incertidumbre y sea capaz de poner de acuerdo a los suyos es curioso lo que está ocurriendo porque nosotros hemos llegado acuerdo importantes

de cerrar pactos entre diferentes y han demostrado una gran incapacidad hasta el momento en la legislatura de cerrar pactos entre iguales

en el sistema de aportaciones entre las diputaciones y el gobierno vasco y tampoco se ponen de acuerdo en la orientación de la política fiscal por tanto yo le pido

determinado no la pregunta que usted me formula es si valoro necesaria una reforma fiscal de fondo para garantizar los servicios públicos y yo le digo

desde esta base valoro necesaria una reflexión y análisis de fondo sobre los resultados de la anterior reforma fiscal también un compromiso de fondo

de fondo para generar las condiciones que conviertan el crecimiento económico en empleo de calidad y también como usted apela un consenso de fondo para preservar la estabilidad y no convertir el tema fiscal en un arma arrojadiza entre partidos políticos e instituciones planteo aplicar

con el acuerdo del cupo es decir un diagnóstico compartido y trabajo técnico discreto medidas concretas con visión

y sobre todo voluntad política de acuerdo compartimos y creemos que es posible mantener los incentivos para mejorar la competitividad y el progreso económico recaudar lo suficiente para garantizar el bienestar social y seguir disminuyendo el fraude fiscal

la postura del lehendakari por lo tanto ha sido clara está escrita en el programa de gobierno y dice impulsar desde el órgano de coordinación tributaria la actualización

para incentivar la actividad económica la innovación y el empleo y para salvaguardar las políticas sociales y los servicios públicos esenciales eskerrik asko

gracias señora presidenta señor lehendakari comprenderá que para nosotros este es un asunto capital y es central también

que ha dado lugar a que podamos aprobar los presupuestos de este año y que nosotros queremos que tenga continuidad pero hay que tener la idea muy clara

y creo que tenemos una oportunidad en un marco de estabilidad en un marco en que ahora tenemos también

que promete durar durante unos años tenemos una oportunidad para orientar una política que garantice

la ampliación de la base de contribuyentes de la riqueza que tiene euskadi eso no se puede hacer elevando la presión fiscal a las familias o apretando más

y habíamos elegido un modelo que apuesta por el crecimiento y que apuesta porque la política social que funciona de verdad es el empleo y que cree que euskadi tiene que crecer y que tiene esa oportunidad y ahí es donde entonces nosotros podemos llegar a acuerdos que funcionen y son acuerdos con una visión

introdujimos una cláusula que hablaba explícitamente de esta cuestión y yo le pido que cumpla y que decía con claridad que en ningún caso se va a incrementar la presión fiscal a las rentas medias y bajas la política fiscal se va a utilizar como una herramienta a favor de la competitividad de nuestras empresas y de que euskadi sea un lugar atractivo para que vengan inversores

del acuerdo que tenemos firmado y le voy a decir más cuando vemos el incremento de la recaudación en los primeros meses de este año y vemos que está subiendo por encima del diez por ciento

está haciendo recuperar a las haciendas vascas la recaudación que se perdió con motivo de la crisis que por tanto está funcionando hay una recuperación clara en el nivel de los ingresos por tanto es necesario ahora en ese

que pensemos la política fiscal como una palanca para competir que por tanto también demos una vuelta a por qué las empresas en el país vasco pagan tipos más altos que en el resto de españa y que lleguemos a la conclusión que es lo que yo le pido a usted señor azpiazu de que piense

y no piense en poner en situación de desventaja competitiva a las empresas en euskadi eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea sí señor alonso para nosotros también ese es un asunto capital y usted ha hecho

y el empleo como actuar con realismo y responsabilidad para garantizar la sostenibilidad de los servicios esenciales

sí se ha producido hasta el momento un incremento de la recaudación y también un aumento de la progresividad del impuesto seguimos compartiendo el objetivo de no hacer recaer el esfuerzo impositivo en las clases medias y bajas

usted sabe que una cosa es el tipo nominal y otra el impuesto efectivo

que incentivan inversión innovación o creación de empleo este es el elemento objetivo real que debemos utilizar para realizar comparaciones homogéneas nuestra conclusión es que la reforma del impuesto sobre sociedades no ha perjudicado la competitividad del tejido empresarial y en este punto traslado

estamos planteando la adopción de medidas que actualicen y mejoren la normativa en vigor y profundicen nuestro compromiso contra el fraude y la elusión fiscal todo ello con la doble finalidad de consolidar la reactivación económica y el empleo así como garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos y todo ello siempre

la propuesta técnica y el consenso en el seno del órgano de coordinación tributaria en el que participan el gobierno vasco y las diputaciones forales eskerrik asko

errekaleor bizirik egotea errekaleor

para que mantenga su condición de empresa vasca de la energía y para que desde su ubicación en euskadi sin que se fragmente continúe ejerciendo de líder del sector energético

el parlamento vasco insta al gobierno español para que mediante la política de regulación promueva

que responda a la defensa y los intereses de los consumidores y alguna cosa más aho batez onartu zen

defendatu zuen proposamena eta hau esaten zuen esta es una proposición para que la máxima

cierre filas en torno a una empresa tan emblemática y tan necesaria para el país como iberdrola creemos que es necesario

a través del cual los consumidores tengan garantizado un buen suministro de calidad a unos costes razonables y con un compromiso

o lo de ofrecer energía a unos costes razonables porque es cuando menos un poco irónico

y la defensa de los intereses de los consumidores y ahora se esté multando y procesando a iberdrola por trampear con los precios de la luz

o abierta la veda de ser muleta de corruptos todo cabe si en dos mil ocho podía haber alguna duda sobre la ética o la honestidad

cuando el juez de la audiencia nacional ismael moreno admite una denuncia de la fiscalía anticorrupción contra iberdrola

en plena ola de frío y con unos índices de pobreza energética rampantes

no hace sino desbordar un vaso que se había ido llenando con todo tipo de prácticas irregulares o ilícitas

antes que empresa vasca es un tiburón globalizado que nada en aguas internacionales y responde como muy bien dice

creo que noventa veces el sueldo de nuestro lehendakari responde digo a su junta de accionistas

accionistas en iberdrola pues son el estado de qatar son el banco de noruega

la mayor empresa mundial de gestión de inversiones panorama honekin

está demostrado que iberdrola ha hecho gala de malas prácticas en los momentos

con más fuerza a la población en algunos casos hay sanciones hay sentencias firmes en otros hay acusaciones presuntas pero

es un gigante que busca el máximo beneficio aprovechando su posición de dominio en el mercado retorciendo las normas en beneficio propio cuando no incumpliéndolas

un día duró la noticia en la prensa un día y un día tardaron varios consejeros de este gobierno en salir a hacer la ola a iberdrola gutxi balitz

a este gobierno sobre qué es lo que va a hacer le he respondido antes previamente al señor martínez y el señor otero se interesa por lo mismo en teoría y en el escrito porque luego de viva voz aquí nos ha contado muchísimas más cosas

exceden este ámbito parlamentario y desde luego exceden la labor del ejecutivo se está centrando en una práctica concreta de una empresa iberdrola

demos espacio a esa práctica concreta sobre la que usted pregunta por qué no pregunta sobre toda la empresa usted pregunta sobre una práctica concreta nos queda

en ese sentido mejora de gestión transparencia desde el catorce al dieciséis con datos la empresa iberdrola mejorando su transparencia y su situación

con unos índices que quizá como al señor martínez a usted tampoco le gusten pero eso está

son datos contrastados y que nos dicen que existe una práctica adecuada en ese sentido aipatzen didazu kalteak baloratzeko hori ere

aldekoak dira es una investigación decíamos del año dos mil trece la que nos ocupa al menos en teoría según la interpelación que usted ha puesto y desde luego es un proceso administrativo un tanto complejo en el que bueno a partir de una serie de datos y de investigaciones que se realizaron por parte

había una resolución sancionadora que en estos momentos la audiencia nacional la propia audiencia nacional ha decidido suspender cautelarmente es decir

esta multa y después ya veremos sino suspender cautelarmente luego

es la información pública que existe y que usted conoce tan bien como yo es un caso judicializado evidentemente

a falta de que esto sea definitivamente resuelto las decisiones concretas y definitivas que existen en la actualidad son dos como usted también conoce la sentencia del cuatro de julio de dos mil doce por la que la audiencia nacional anula

se anula la única que existía y otra decisión de la fiscalía de bizkaia para archivar fue de febrero de dos mil dieciséis

dos sentencias firmes y las dos a favor de iberdrola y la otra suspendida eso es la situación en la que nos encontramos y esos son los hechos concretos

nos está hablando como desde luego formáramos parte del accionariado de

ni el gobierno formamos parte de ese accionariado y por cierto ha utilizado usted una expresión que hacía referencia he entendido no sé

o al partido nacionalista vasco que hablaba de muleta de corruptos

si entiendo de una forma muy determinada es muy grave la acusación que usted nos hacer y esa acusación debería estar basada

prefiero no seguir con este tema aipatzen duzunean gainean autokontsumoa lekurik okerrena daukagula

gaurko kasua da la gota que colma el vaso eta sekuentzia bat egingo dizut dos mil seis

dos mil siete sanción de la comisión nacional de la competencia de treinta y ocho millónes por abuso de posición dominante dos mil nueve

por limitar el precio de la electricidad según iberdrola dejó de ganar trescientos treinta y seis millónes de dólares y le reclamó seiscientos setenta y dos dos mil nueve

por negar el acceso a sus competidores al sistema de información de puntos de suministro dos mil nueve

al cero por ciento dos mil nueve el señor mataelefantes de españa inaugura en letonia una central de ciclo combinado construida

dos mil diez salta el escándalo detienen cinco directivos de acusados de recibir sobornos de iberdrola de más de siete millónes de euros

hay casos similares en albania en bolivia en brasil en siria dos mil diez iberdrola paga el impuesto de sociedades en las arcas vizcaínas segundo año consecutivo al cero por ciento dos mil doce

por traspasar clientes entre sus comercializadores dos mil trece el

aquí no pasa nada dos mil catorce la famosa denuncia de facua por cobrar a los usuarios un plus por contadores inteligentes sin prestar los servicios que dan estos contadores dos mil quince multa de la cnmc veinticinco millónes por infracción muy grave manipula los embalses

beneficio de la empresa veintiuno millónes daños para las personas usuarias ciento cinco millónes de euros dos mil dieciséis castilla la mancha iberdrola sancionada uno coma cinco millón de euros

dos mil dieciséis intermon oxfan publica un estudio sobre paraísos fiscales de empresas españolas

sesenta y nueve filiales en paraísos fiscales sesenta y nueve erotismo capitalista dos mil diecisiete enero se va aclarando la mafia eólica de castilla y león entre dos mil cuatro y dos mil nueve se da la trama corrupta la presunta

presuntamente otra vez iberdrola paga cuarenta y uno millónes de euros a alberto esgueva

el organismo que otorgaba los permisos y mi fuente aquí es la agencia tributaria veintiuno personas acusadas de prevaricación blanqueo delito fiscal y tráfico de influencias entre ellas

el modus operandi mandar una legión de comerciales a destajo subcontratados llamado puerta a puerta y engañando a clientes vulnerables y personas ancianas prometiendo descuentos en la luz y haciendo nuevos contratos con los que terminaban por pagar más

según declaraciones de los propios comerciales marzo diecisiete el supremo condena a iberdrola por ocultar información de dos mil diez y dos mil once sobre cortes de luz por impago en madrid iberdrola cortó la luz a más de trescientos cincuenta mil clientes en el estado en esos dos años más bi mila hamazazpi iberdrola absorbe la filial iberinco

resumo electropolución abuso de posición dominante negar acceso de información al regulador ingeniería fiscal corrupción competencia desleal cobrar peajes

qué tiene que pasar para actuar y alejarse de iberdrola señor urkullu para rematar mayo de dos mil diecisiete la semana pasada

en los medios pero al día siguiente ha desaparecido buena muestra de lo que significa tener la sartén por el mango al día siguiente pedro azpiazu declara

a las reglas del juego y arantza tapia dice tenemos que ser respetuosos con los tiempos y ver las conclusiones poco que añadir señorías la última

a una frase a una frase que se atribuye erróneamente por cierto

es un hijo de puta pero es nuestro hijo de puta pues eso a ver si toman medidas ya eskerrik asko otero jauna

su interpelación dice lo que dice usted luego aquí sale y dice lo que se le ocurre me parece fantástico ahora bien usted y yo estábamos hablando de exactamente lo que ha ocurrido con la entrada de la guardia civil y cómo nosotros vamos a actuar eso es lo que decía y yo a eso le voy a responder

no corresponde ni a este parlamento ni a este gobierno vasco y es verdad que como no puede ser de otra manera presunción de inocencia porque usted también habla de

no podemos ni actuar ni tomar ninguna decisión antes de que se resuelva y después de que se resuelva entiendo que igual nosotros tampoco

pero en este caso estábamos hablando de una muy concreta eta guztiok daukagu interes handia

esto acaso es la cara cien del acuerdo presupuestario partido popular pnv

alonso tengan ustedes una cláusula con ustedes aunque claro el señor alonso en la cláusula escribe lo que le da la gana y luego viene a decir aquí que hay que bajar el impuesto de sociedades

y eso es lo que le están pidiendo los empresarios bueno no los empresarios sino confebask que

confebask bajar el impuesto de sociedades y el impuesto de patrimonio con la excusa de mejorar la ventaja competitiva de las empresas hay que tener

eso es lo que tienen esas personas mucho morro señor lehendakari porque no quieren hacer la aportación que tienen que hacer a la sociedad y quieren recibir todo lo que tienen que recibir del gobierno vasco y de las diputaciones y ahí tenemos el bunker de bizkaia no tengo que recordarle dónde fue el diputado general de bizkaia y qué planteó en inglaterra más o menos

era bizkaia para los nuevos empresarios aquellos que con el brexit se puedan ver

la verdad señor lehendakari esperaba algo más de usted esperaba que por lo menos saliera aquí a defender la postura de su consejero de economía porque el señor azpiazu lo ha dicho

azpiazu jaunaren hitzak dira y se lo hemos dicho en los presupuestos se lo hemos dicho

aquí diciéndoselo no puede ser no puede ser y ustedes niegan la mayor ustedes niegan que los servicios públicos hayan ido a peor

ustedes niegan que haya menos inversiones públicas para el bienestar de la sociedad y eso es lo que está pasando y ustedes firman un acuerdo con aquellos que niegan sistemáticamente

para eso tienen que hacer una reforma fiscal de verdad una reforma fiscal con profundidad y no un análisis del fondo de la reforma fiscal no una reforma fiscal de fondo

y lo que si quiere podremos hacer entre todos y todas pero evidentemente de la mano del partido popular

legebiltzar buru andrea señora pinedo le repito lo que he contestado antes también

la innovación y el empleo y para salvaguardar las políticas sociales y los servicios públicos esenciales y se lo he dicho también al señor alonso desde el máximo consenso posible y eso consenso una vez de que salga la directriz desde el órgano de coordinación tributaria también se lo propondremos a eh bildu

gure programan onartu dugunarekin el gobierno vasco en su conjunto está de acuerdo en el beneficio de la estabilidad y la certidumbre fiscal

en que las nuevas medidas tributarias deben contribuir a avanzar en dos objetivos dos sostener las políticas públicas

para que creen más empleo y de más calidad y se lo he dicho también al señor alonso

en referencia al impuesto de sociedades una cosa es el tipo nominal y otra cosa es el tipo efectivo más empleo más recaudación más sostenibilidad futura para los servicios

trabajaremos en el órgano de coordinación tributaria y ofreceremos a todos los grupos la propuesta

comenzar confesándole que nos sorprendió un poco que en un clima de entendimiento y de acuerdo en un clima podremos convenir que positivo en virtud del cual su gobierno

en el que el grupo parlamentario que es el del sustenta llega a acuerdos presupuestarios con el mío en el que el grupo

parlamentario popular su gobierno decidiera en ese momento y en ese clima y en ese contexto participar en una consulta independentista a través de la presencia de la señora tapia

y no sé si tan siquiera usted lo conoce pero sí estamos verdaderamente interesados en conocer

supone un cambio de rumbo supone marcar posición fijar una nueva posición por parte de su gobierno a la hora de afrontar estos temas gracias

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señor sémper ha comenzado usted su intervención aseveración una afirmación que es absolutamente fuera de lugar mire la posición institucional del gobierno vasco se expresa en nuestro programa estamos hablando de una consulta popular de iniciativa social no institucional y no el gobierno vasco ha decidido nada cada persona ha decidido su participación

yo respeto la organización de un acto legal democrático y respetuoso organizado por una asociación legal democrática y respetuosa vivimos en un país en el que las ideas políticas pueden ser defendidas en libertad

nadie ha cuestionado el objetivo de la asociación gure esku dago ni la organización del acto del día siete de mayo el delegado del gobierno español lo ha cuestionado y me llama la atención que lo haga usted señor sémper el acto transcurrió con absoluta normalidad y sirvió para que las personas que participaron

y yo respeto la decisión de esas personas incluida arantxa tapia consejera a la sazón eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna sémper jauna zurea da hitza

y entender o intentar entender porqué su gobierno o sus consejeros toman adoptan determinadas decisiones y lo razonable es que vengamos aquí a interpelar usted

claro la señora tapia o cualquier miembro de su gobierno perdona señora tapia por las menciones expresas

hay una representación institucional que ustedes ostentan que además es indelegable por supuesto pero que tampoco se puede uno desprender de ella en función de las circunstancias y los momentos

para participar en cualquier cosa que le convenga siempre y cuando sea dentro de la legalidad pero cuando uno ostenta una responsabilidad de gobierno primero no representa a su partido político

pero representan al conjunto de la ciudadanía vasca y esto es algo que no podemos obviar y que su gobierno y sus consejeros no pueden obviar y lo que

es que desde la moderación desde la voluntad y la capacidad de acuerdo y de entendimiento es como ser capaces de progresar y de avanzar si nos perdemos en vericuetos si nos perdemos en otro tipo de debates e iniciativas que van a tensar

la política y la convivencia en euskadi eso será un mal negocio para el conjunto de los vascos porque afrontamos inmensos e importantísimos retos como sociedad retos a los que no solo estamos llamados los vascos sino que está llamado prácticamente occidente

tenemos grandes retos que afrontar como la globalización y lo que eso supone para nuestras empresas para nuestra economía y para nuestras familias

tenemos que ser capaces de abordar importantes retos como la competitividad

no nos perdamos en otros caminos y en otros debates y en otras historias no lo haga su gobierno

porque una vez se lo dije y permítame que se lo recuerde señor lehendakari hay estrategias hay cálculos que siempre sale mal cuando se trazan estrategias y cálculos sobre cuestiones que a uno se le escapan de las manos miren en cataluña lo que ha sucedido mire lo que la ha pasado el gobierno en cataluña y mire cuál es el clima de convivencia y cuál es el clima de convivencia en cataluña

para avanzar juntos para crecer juntos como sociedad independientemente de las siglas que unos y otros queramos defender

otro grupo políticos y entonces hace falta hacer ese tipo de gestos

y esta sociedad está necesitada de serenidad de acuerdo y de mucha certidumbre

si hablamos de actos en los que participan de forma privada miembros relevantes de partidos o de gobiernos o cargos públicos podríamos escribir un libro y cargos de su propio partido señor sémper seguro que tendrían papeles estelares

yo le voy a decir todo seguido para que no se malinterprete

la posición del gobierno vasco está clara y está recogida en nuestro programa no tengo nada más que añadir más allá del respeto a una iniciativa social y a una decisión y yo respeto la decisión de las consejeras y de los consejeros de ambos partidos políticos como las decisiones mías que participo en actos de partido político

o no participar hacer o no hacerlo y déjeme decirle una cosa más

en españa puede hablar de referéndum independentista como dice en la justificación de referéndum independentista y en la pregunta lo dice así señor sémper y nadie nadie le va a pedir cuentas el día siete de mayo en zumaia no se celebró ni un referéndum ni siquiera un pseudoreferéndum

señor sémper la prueba es que ni se ha recurrido ni se ha prohibido señor sémper los excesos no llevan a ninguna parte en ningún orden de la vida incluida la política

décimos tener a las ideas y a las libertades siempre que se expresen en el marco de los principios democráticos básicos yo le invito a aparcar sobreactuaciones y a trabajar en la ponencia de autogobierno para intentar alcanzar un acuerdo interno y un pacto con el estado que satisfaga las aspiraciones y demandas de la sociedad vasca y le aseguro señor sémper

le preguntábamos sí le parecía justo el acuerdo y el decreto que el partido nacionalista vasco que sustenta su gobierno respaldo ayer el decreto de la estiba

formaba el apoyo del partido nacionalista vasco al decreto de la estiba del partido popular parte

han llegado tanto en la cámara de gasteiz como en el congreso de españa así se entendería mucho mejor la cronología de los acontecimientos en el marco del debate de presupuestos de esta comunidad y por qué el señor azpiazu se inventó se sacó de la manga unos plazos

de que hubiera que votar por primera vez el decreto de la estiba en el gobierno de madrid

apoyando al pp en la precarización en la privatización de servicios en la destrucción de empleo y de calidad del empleo quería tener la garantía de que el pp iba a aprobar los presupuestos de esta comunidad sabíamos muchas cosas sobre su doble acuerdo presupuestario con el partido popular sabíamos que era una traición a cataluña la próxima vez que usted vaya a cataluña le invitará la señora arrimadas o el señor albiol no desde luego

poco menos que vendido sabíamos que ese acuerdo blanqueaba la corrupción y poco tardó el señor ortuzar en decir que la corrupción del pp era cosa del pasado

de la semana pasada sabíamos que era un salvavidas a rajoy que les hace a ustedes cómplices de las políticas del partido popular en madrid porque dan estabilidad a ese gobierno tal y como usted

públicamente y les hace por tanto corresponsables de los recortes en el ámbito social y nacional que ese gobierno perpetre de ahora en adelante y sabíamos también que era un fraude a la ciudadanía porque ayer misma esta cámara expresó su rechazo al aspecto fundamental que ustedes han acordado

quedó claro de una manera evidente que una mayoría de la sociedad rechaza ese presupuesto y rechaza los acuerdos a los que le dan pie ahora sabemos también que había otro tipo de acuerdos sabíamos que había acuerdos para precarizar el empleo y para precarizar

al partido popular para que hiciera las cosas como bien quisiera porque les dieron el apoyo al decreto de la estiba el dieciséis de marzo y se lo han vuelto a dar ahora sin incluir ningún elemento de negociación en ese apoyo como han hecho en otras cuestiones era un cheque en blanco porque estaba asociado a otras cuestiones bagenekien europatik

ayer se vio en el congreso de madrid una gran federación española de derechas el partido popular ciudadanos upn foro asturias

liberalización pura y dura que tanto les gusta a las derechas le habéis dado un cheque en blanco dentro de este giro a la derecha

para liberalizar a su manera para precarizar ahora los trabajadores y trabajadoras solo les queda la lucha para defender sus condiciones de trabajo y en esa lucha evidentemente tendrán a su lado
como siempre a eh bildu y en frente como casi siempre al pnv junto a la patronal eskerrik asko casanova jauna lehendakari jauna zurea da hitza

señor casanova sabíamos sabíamos sabíamos nosotros sabemos que para solventar sus problemas internos señor casanova ustedes tienen la estrategia de siempre también otros tienen la misma estrategia últimamente pero ustedes particularmente de siempre tienen la estrategia como hoy se refleja también en una entrevista de una representante suya en el congreso de los diputados dialogar sí pero negociar no

por dialogar si tenemos que llegar a una negociación nos manchemos las manos

para que nos salve a nosotros las cuestiones vengan ustedes sigan viniendo ustedes

a hacer que nosotros hagamos por resolverles sus papeletas con quienes ustedes denuncian que negociamos

negoziatu eta itundu ahal izango dira señor casanova hace un mes respondía a esta misma cuestión en esta misma cámara exhortando a los agentes públicos y privados implicados a mantener el diálogo y la negociación la aprobación ayer del decreto trata de impedir la multa europea

la patronal del sector y la administración española les compete pueden y deben hacerlo para garantizar el mantenimiento del empleo las ayudas y las mejoras al sector reitero nuestra posición respaldo a los derechos laborales de los trabajadores de estiba fomentando los acuerdos en la negociación colectiva aplicación de la sentencia del tribunal de justicia de la unión europea de la forma menos lesiva para los intereses de los trabajadores

a favorecer la estabilidad laboral aplicar indemnizaciones en los empleos no subrogados y ampliar las ayudas para las prejubilaciones ustedes nada cero

gure helburua zehatza izan da langileen lan baldintzak lehenestea vamos a seguir reivindicando la transferencia también
de los puertos tal y como hemos hecho esta misma semana junto al presidente de la comunidad valenciana algo que usted no ha hecho eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

sabe señora consejera que en los últimos años la unión europea esta que ustedes dicen que es inflexible viene autorizando a los estados miembros pagar un anticipo

ustedes nunca han autorizado estos anticipos es más se han negado a hacer las gestiones

no solo no adelantaron los pagos sino que lo retrasaron más de seis meses con los consiguientes perjuicios para el sector primario ni en el dos mil catorce ni en el dos mil trece
señora consejera es voluntad del gobierno agilizar los trámites para hacer efectivo el adelanto de pago de las ayudas pac de bi mila hamazazpi

eskerrik asko presidente andrea señora lópez de ocariz de este tema hemos hablado también en otras ocasiones

una apuesta decidida dotar de la mayor eficiencia posible a la estructura administrativa de la gestión de la pac no únicamente en esa gestión sino también globalmente en lo que se refiere al área de agricultura en relación a la tramitación

sí es cierto que en el periodo de programación dos mil quince dos mil veinte hemos tratado de mejorar la eficiencia de los diferentes niveles administrativos que suponen una cercanía al sector pero en determinadas circunstancias

y usted también recordará que se lo comenté el pasado año hemos decidido asumir el desafío de contar con una estructura informática propia que

y de responder de una manera más eficaz a las necesidades del sector todo ello ha conllevado sí es cierto un cierto retraso unos problemas unas dificultades en poner en marcha de forma integrada coordinada y conjunta esta herramienta informática y

dos mil quince a treinta y uno de diciembre se había pagado alrededor de veinte millónes de euros es decir un cuarenta y cuatro por ciento del total que había que abonar

pero abordando las necesidades del sector como usted bien afirma la previsión

que hay que realizar en la campaña de dos mil diecisiete y la flexibilización de la unión europea en determinados aspectos en este sentido el pasado trece de enero de este mismo año del dos mil diecisiete hemos aprobado por unanimidad

realizar los trámites necesarios con esa herramienta y administrativamente para realizar el pago de esos anticipos en este dos mil diecisiete por tanto mejoraremos tanto los

del año como esos anticipos que había sido imposible realizar en pasados ejercicios eskerrik asko eskerrik asko

pagos de anticipos tan importantes tan necesarios porque mire solo en álava

que cobran una renta de pac anual media de veinticuatrocero veinticincocero euros que un anticipo del setenta por ciento

que si eso lo multiplicamos son treinta y cuatro millónes de euros que no es lo mismo pagarlos en octubre que pagarlos en diciembre porque con ese dinero pueden afrontar

y los ganaderos la compra de piensos etcétera etcétera que si tienen que ir al banco les cuesta

esto no es gratuito porque claro señora consejera cuando usted el otro día pedía

creo que lo que ustedes estaban haciendo no correspondía con esta petición que ustedes hacían porque como le digo lo que ustedes han hecho hasta ahora ha supuesto un perjuicio importante para el sector primario

y eficientes y deben de garantizar a nuestro sector primario

porque durante algunos años hemos sido los únicos que no hemos abonado el anticipo por lo tanto señora consejera

era muy costoso hacer eso muy costoso será para todos

de cuatro años por lo tanto señora consejera cuando yo el otro día le leía unas declaraciones suyas que decía que pedía

que se adapte a las características de cada territorio con un esquema más duradero y no sujeto a reformas permanentes y yo me preguntaba pide flexibilidad

estructuras que no se muevan no lo entendía para luego pedir una política agraria común propia

se van a hacer ustedes con toda la política agraria común es común con quién con usted mismo

hacían y suponía o parecía suponer que

y que me alegra mucho que estos anticipos se vayan a hacer pero que sean conscientes de que tenemos que mandar mensajes más ajustados a la realidad

estamos de acuerdo con usted con lo relativo a los anticipos pero sin embargo era crucial para nosotros tener una herramienta común para todas las administraciones y cuando el diputado foral

a lo costoso no hacía referencia a lo costoso económicamente sino a lo costoso en la forma de organización hemos terminado el proceso y hemos adoptado la decisión por tanto

se podrá utilizar esa herramienta de anticipos que el año pasado fue del setenta por ciento porque fue un año excepcional lo sabe usted también

de alguna forma se ha permitido el setenta por ciento cuando habitualmente es alrededor del cincuenta por ciento sea lo que sea que decrete la unión europea se podrá aplicar

cuando hacemos referencia a una política subsidiaria y flexible estamos refiriéndonos

de acuerdo con los parámetros comunes pero adaptada a lo local y usted sabe perfectamente

y hacía referencia a tres aspectos uno desde luego que tenga un carácter permanente en segundo lugar que tenga en consideración a las explotaciones familiares

estará de acuerdo en que así sea que se nos considere por las características de nuestros terrenos que hay una agricultura de montaña a la que hay que atender de forma específica y sobre todo que se dé prioridad a todos aquellos que viven prioritariamente de su explotación agraria

esos otros que tienen una explotación agraria inactiva y que reciben recursos sin ninguna necesidad eso es a lo que nos estábamos haciendo referencia y probablemente usted estará de acuerdo conmigo eskerrik asko

sailburuok el pasado uno de mayo la consejera artolazabal

textualmente hay que apoyar el desarrollo de nuestra juventud y de que nos nuestros jóvenes trabajen en europa con todo el potencial de sus capacidades

les va a aportar mucho cuando regresen a sus ciudades de origen enriqueciendo a cada país y con ello a toda la unión europea una frase para enmarcar

pero muy importante matiz que en ocasiones parece que se le olvida a usted señora consejera y es que a veces no parece diferenciar muy bien entre el salir a trabajar

que la situación de los y las jóvenes vascas en euskadi es la óptima y que ven el hecho de trabajar en europa como una oportunidad o como una obligación debido
a la falta de oportunidades en nuestra comunidad autónoma eskerrik asko bollain jauna erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

trabaje en europa constituye una oportunidad para su desarrollo como persona una oportunidad para poder estudiar

una oportunidad para poder trabajar en culturas empresariales diferentes a la nuestra una oportunidad para poder adquirir experiencia laboral en empresas punteras y líderes

es importante que la gente joven se desplace para ampliar experiencias y buscar oportunidades

son muchos los jóvenes vascos que salen fuera como también lo hacen jóvenes escoceses que van a paris alemanes que van a milán holandeses que van a berlín entre otros muchos y también son jóvenes las alsacianas los de múnich los de estocolmo los de gales que vienen a euskadi

y eso es bueno a día de hoy con las estimaciones de erasmus y de

en dos mil catorce casi millón y medio de estudiantes de educación superior que estudiaban en los estados miembros de la unión provenían de otros países es lógico

es la de intentar que siempre tengan en euskadi un referente para desarrollar sus vidas

formativos atractivos presencia de empresas avanzadas y ofertas laborales de calidad

y de recuperación del empleo si bien todavía no hemos alcanzado los valores previos a la crisis

el empleo de nuestros jóvenes con calidad y dentro de nuestras empresas es uno de los objetivos principales de este gobierno y para eso vamos a seguir trabajando así pues
las oportunidades de salir al extranjero son siempre bienvenidas para nuestros jóvenes y para nuestra sociedad eskerrik asko

señora artolazabal lo que no es lógico es que nuestros jóvenes se vean obligados

fuera de nuestra comunidad autónoma creo que es innegable que un porcentaje muy alto de las salidas a trabajar en europa de nuestros jóvenes son debido a la falta

con un paro juvenil cercano al veinte por ciento y no podemos tolerar que estas salidas sean por obligación y no por voluntad propia

y la tasa de actividad señora consejera como usted bien sabrá la tasa de actividad en la juventud ha descendido paulatinamente en los últimos años al pasar en dos mil seis del cincuenta y nueve coma dos por ciento al cuarenta y ocho coma cuatro por ciento en bi mila hamazazpi

que un veinte por ciento eso es lo que no es lógico y a buen entendedor señora consejera pocas palabras bastan el informe juventud necesaria

millónes de euros las pérdidas que en los próximos diez años supondría que continúe

de miles de jóvenes cantidad resultante simplemente de sumar el gasto que ha invertido el gobierno en educación

que existe cuando nuestros jóvenes trabajan en otros territorios ni más ni menos

millónes de euros decía usted señora consejera que el bagaje de trabajar en europa les va aportar mucho a los jóvenes cuando regresen a sus ciudades de origen y es verdad si no fuera porque lamentablemente no pueden regresar no pueden regresar porque no tienen como labrarse un futuro en euskadi

de las pocas oportunidades que encontramos jóvenes como yo en euskadi muchos jóvenes nos tenemos que marchar y remarco nos tenemos que marchar hablo en primera persona artolazabal yo hoy en día soy un afortunado sin duda pero mis amigos y mis amigas han tenido que salir y sí usted les pregunta por qué algunos te dirán que por voluntad propia pero ingenieros fregando platos en berlín hay a patadas

no podemos permitir ni un momento más que lo que nosotros invertimos en educación para el futuro de nuestro pueblo para que nuestros jóvenes puedan labrarse un futuro para que nuestros jóvenes dignamente no podemos permitir que la generación más preparada de nuestra historia sea
la mano de obra barata de la señora merkel eskerrik asko bollaín jauna

presidente andrea usted dice que se ven obligados a salir y que no pueden regresar

que bueno obtenidos además del observatorio vasco de la juventud que demuestran

solamente el siete coma nueve por ciento de la juventud encuestada entre los dieciocho y los treinta y cuatro años creía

ese porcentaje se ha visto reducido en los últimos años fruto del descenso de la tasa de paro que estamos experimentando y de la gestión que realiza este gobierno

ha supuesto el cuarenta y tres por ciento y es superior a la registrada en el dos mil once y en el dos mil trece por tanto la tasa de retorno de los vascos de los jóvenes vascos que salen al exterior está aumentando y están volviendo que nuestros jóvenes vayan al extranjero para adquirir experiencia laboral o formarse y ampliar conocimiento de idiomas y crear contactos es bueno

esa experiencia es buena y especialmente cuando dentro de sus objetivos está el retorno a casa a nuestras empresas y a nuestra sociedad ese retorno de la juventud y de su talento es lo que enriquece a este país

estas son políticas reconocidas y que ofrecen una gran oportunidad de aprender de las diferentes culturas prácticas empresariales y quiero destacar que la mayoría de la juventud que ha tenido una experiencia laboral en el extranjero tiene estudios superiores habla inglés y está actualmente trabajando empleos de calidad no hace mucho en las jornadas que estábamos celebrando en una universidad vasca los propios estudiantes comentaban las oportunidades que veían en pasar una temporada fuera insisto no podemos estigmatizar la movilidad internacional
los registros administrativos indican que en los último años se ha producido un pequeño descenso en el número de personas jóvenes que han salido y las que han tenido que volver eskerrik asko artolazabal andrea

berriz ere bueno señor azpiazu como usted bien sabe

la recaudación por el impuesto de sociedades sigue en caída libre hemos podido leer

sobre la necesidad de actualizar el impuesto de sociedades en sus propias palabras

como tienen muchos países europeos totalmente de acuerdo y desde elkarrekin podemos también tenemos claro cuál es el camino y es necesario aumentar la presión fiscal en el impuesto de sociedades

es concreta y directa señor azpiazu defenderá el gobierno vasco y en particular usted

aumentar la presión fiscal del impuesto de sociedades contrariamente a lo que el señor rementeria ha firmado recientemente eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

tanto por el modo de justificar su pregunta como por el modo de que esta ha sido formulada hoy es evidente que usted conoce sobradamente lo que este consejero y este gobierno han venido manifestando

que permita desarrollar las políticas públicas de carácter social y de reactivación económica y creación de empleo en todos los niveles institucionales

en relación al impuesto de sociedades ni sobre ningún impuesto en concreto es extemporáneo aventurar contradicciones como

yo creo que ver supuestas posiciones encontradas como ha sido también

creo que estaríamos cometiendo un error dado que en este momento como ha dicho también el lehendakari estamos abordando

a la reforma que se planteó el año dos mil trece baliozko iritzi kontrajarriak begiratzea gauden unean

desde los ámbitos competenciales de cada institución como no puede ser de otra forma lo décimos

impulsaremos desde el órgano de coordinación tributaria la actualización de la normativa fiscal precisa y esto

de la actividad económica no nos engañemos yo creo que el apoyo a la economía real es fundamental las empresas

que han contado cuentan y contarán con el apoyo de este gobierno eskerrik asko azpiazu jauna

señor azpiazu dice usted que no se va a repetir pero esto es una sesión de control al gobierno y yo le he hecho una pregunta clara a ver si defenderá usted ante el órgano de tributación

el lehendakari también habla hoy de actualizar pero cuando habla refiriéndose al señor alonso habla de actualizar

habla de una reforma fiscal profunda hoy en día sabe que

hace ocho días exactamente usted respondía esto mismo a unas palabras de cebek

en dos mil dieciséis lo aportado mediante impuestos directos del total del treinta y cinco coma cinco por ciento del total de la recaudación lo pagan las rentas del trabajo

lo pagan las rentas de capital y los beneficios la recaudación del impuesto de sociedades supone

recaudación de europa junto a lituania y a estonia datos que consideramos graves y que consideramos que solamente una recaudación justa de los más pudientes sería factible

los impactos de la crisis sobres las clases más vulnerables

para que este fuera más atractivo y así ser más competitivos unos ajustes más atractivo más competitivo en definitiva aligerar la factura de los empresarios como decía la patronal a costa del resto es justo lo contrario lo que usted decía y destacaba el ocho de febrero cuando

deben poner todos los instrumentos que tenemos en nuestras manos en materia de fiscalidad para lograr incrementar la recaudación y que teniendo en cuenta que la presión fiscal en el impuesto de sociedades en euskadi decía usted no es mayor que en españa y es menor que en europa

y el instrumento no es precisamente ir a rogar al señor rementeria sino que reside en esta cámara entonces sus palabras qué son postureo o realidad

si no nos tendrá a su lado para caminar y conseguir una subida en el impuesto de sociedades por eso

de una manera distinta usted señor azpiazu está de acuerdo con elkarrekin podemos en que hay margen como más de una vez ha declarado y en que es de justicia social subir la presión fiscal

ejercida por el impuesto de sociedades o por el contrario tal y como ha dicho hoy el señor alonso en el pacto presupuestario

el gobierno vasco se comprometió a no subir los impuestos o de otra manera va a mantener la posición de incrementar la presión fiscal

o por el contrario va a ceder a las presiones de quienes en el pnv hacen de portavoces del lobby en la patronal de cebek y de confebask como el señor rementeria

yo ya no tengo una posición como para andar de postureo creo que tengo una posición de responsabilidad que es la que voy a ejercer desde luego

será la que tenga que ser para cumplir los objetivos que deseamos compartimos en ese sentido los objetivos

debe perseguir y ahí está recogido también en nuestro programa de gobierno le completo la frase que antes le he leído en parte y dice impulsaremos desde luego la tributaria la actualización de la normativa fiscal precisa

la innovación y el empleo y para salvaguardar las políticas sociales y los servicios públicos esenciales compartimos que ello ha de hacerse concitando el mayor grado posible de consenso institucional en el seno

como perfectamente lo ha dicho el lehendakari esta mañana y compartimos que cualquier modificación

no cabe hacer una reforma tributaria un cambio tributario o como quiera denominarse a espaldas de las instituciones forales que son las competentes

tienen que llevar las medidas a las juntas generales que han de ser aprobadas con el apoyo de los junteros yo creo que estas son las reglas del juego y no podemos saltarnos las reglas del juego

por lo tanto insisto compartimos los objetivos compartimos la necesidad de alcanzarlos desde el consenso institucional y político y compartimos que se haga también de forma armónica en el conjunto del país y sea en bien de la suficiencia financiera interinstitucional mejorando el sistema vasco del bienestar y reactivando la economía y creando empleo

por tanto seamos rigurosos con lo que estamos tratando difícilmente puede afirmarse

cuando la mesa sectorial representa a uno de los colectivos y no a todos los llamados a la movilización por los sindicatos pero sí señora ubera se anunció dicha mesa y se hizo antes de que hubiera ningún llamamiento a la huelga sí repito antes de que las huelgas de este mes fueran convocadas

es de fecha del doce de abril es más conoce usted el porqué de la convocatoria

aspectos de gran relevancia para nuestro profesorado y es que ya en la anterior mesa sectorial celebrada en enero se señaló que en breve se celebraría otra a la que la administración acudiría con datos y propuestas y es que señora ubera desde el comienzo de la actual legislatura se ha convocado a los sindicatos

funcionarios docentes dos comisiones de planificación catorce de febrero y quince de marzo de este año

y el del cuatro de mayo laborales docentes y educativos dos mesas paritarias veinticuatro de noviembre del dos mil dieciséis y veintisiete de febrero de este año laborales docentes de religión una mesa negociadora veinte de febrero de dos mil diecisiete

un total de diez comisiones y mesas de negociación además de varias mesas territoriales desde el inicio de la legislatura inkomunikazioa cree usted que no existe voluntad por parte de esta administración de negociar

bajatik beste lan batzuk burutzeko bajatik eta abar izanda ere como venia señalando seamos rigurosos con la información

el compromiso de convocar plazas a ope durante la presente legislatura con un número como mínimo

en todo caso habrá que ver si la legalidad permite avanzar más aun y así lo haremos si es posible siempre lo hemos afirmado

siempre y cuando exista seguridad jurídica para ello se adquirió también el compromiso de explorar las nuevas vías que se están barajando como el acuerdo entre el ministerio y los sindicatos

pero también está claro que se habló y se debatió sobre otros temas aunque quizás no se llegaran a acuerdos y es que la reunión duró más de dos horas señora ubera insisto le parece a usted que no hubo voluntad negociadora yo creo que en la base de toda negociación está eso la voluntad

todos hemos de reconocer los límites de la negociación el principio de realidad y es que no se puede negociar lo que no está en manos de uno no se puede negociar salvo con la verdad y la realidad nuestras verdad y nuestra realidad la de nuestras de mesas de negociación se atiene a una premisa y es la de no engañar a nadie

a nuestro profesorado motor principal del cambio y del éxito de nuestro sistema educativo no podemos obviar la existencia de unos límites legales como la tasa de reposición al igual que no podemos obviar

de nuestras competencias tanto educativas como de naturaleza organizativa ante la administración del estado y ante los tribunales no podemos obviar el recurso en defensa de nuestras ratios de nuestras horas lectivas de nuestras sustituciones o más aun el recuso de inconstitucionalidad

y cuando hablamos de mejorar nuestro propio sistema educativo una de las claves principales de este proceso es la evaluación

y en ello estamos trabajando y para ello lo primero es contar con la colaboración de todos los agentes

a través de llamadas a la insumisión no creo que esta sea la vía de la negociación por último quiero subrayar que la situación que estamos viviendo en la enseñanza no favorece a nadie

la vida de nuestras familias de verdad creo que la educación de nuestros hijos e hijas merece que sigamos sentándonos a hablar a acercar posturas a explicarnos

a mi parecer se está informando a la sociedad de manera errónea en algunos aspectos me gustaría suponer que no intencionadamente comenzaré por detallar los datos de seguimiento de la huelga

y lo haré con los datos oficiales recogidos por los propios centros educativos y coordinados por el servicio de inspección

pues bien la incidencia de la huelga del dieciséis de mayo se sitúa en lo que la administración educativa se refiere en nueve mil setecientos sesenta y dos profesores y profesoras de un total

si incluimos también al personal de educación especial y colectivo de cocina y limpieza ese

este es el dato definitivo de la huelga después de haber analizado el cien por ciento de los centros educativos

la cuestión es cómo es posible que se barajen unas cifras que casi duplican este porcentaje cuando el análisis escrupuloso técnico y con el tiempo debido de los datos

otro dato sobre el que también se debate y es el de la interinidad que como he dicho asciende al veintiséis coma nueve por ciento en el colectivo de docentes

cómo es posible que se barajen porcentajes que superan en diez puntos el cómputo de interinidad no será que se computan como tal las sustituciones por decir algo

cómo es posible que pida que deroguemos la lomce cree usted que puede el gobierno vasco este parlamento

obviamente no nos encantaría pero no está en nuestras manos no confundamos a la sociedad oso ondo dakizu

del consejo escolar son destacables los siguientes datos que conviene recordar euskadi mantiene tasas absolutas de financiación por alumnos superiores a la mayoría de los países europeos se invierte por alumno y alumna nueve mil ochocientos sesenta y ocho euros cuando la media europea es de nueve mil trescientos cincuenta y tres euros y estas distancias son aún mayores

dos mil trece del informe del consejo escolar del estado igualmente deberíamos recordar que nuestro sistema de becas ha sido recurrido por el ministerio de educación español por excesiva respecto a los ratios por aula señalar que euskadi es la comunidad autónoma con menor ratio alumnos por aula y menor ratio alumnos por profesor

y creemos necesario negociar y acordar gure ustetan gure hezkuntza sistema zaindu beharrekoa da

andrea compañeros compañeras parlamentarias consejeros

egun on guztioi a veces en políticas de salud

es el problema que voy a abordar hoy que es la relación de la falta de pediatras en los centros de salud consultorios y ambulatorios

es un problema con más de diez años de recorrido que ni está solucionado ni por lo que sabemos tiene vías de solución en estos momentos

en estos momentos no es un tema nuevo es un tema recurrente

eché un vistacillo para que no nos digan luego estos de podemos vienen nuevos y no se enteran cómo no nos vamos a enterar si estamos en la calle

la parlamentaria laura garrido la exparlamentaria blanca roncal del psoe el exparlamentario gorka maneiro la exparlamentaria andrea antía del pnv cuando tenía en frente al consejero rafa bengoa

el mismo problema problemas de pediatría o problemas de dimensión de plantillas en los centros de salud

no ha habido ninguna respuesta bueno sí ha habido una respuesta en el dos mil diez se contrató una consultoría externa

es un pequeño lío en el dos mil once se nos prometió la presentación de propuestas hasta hoy yo entiendo que la consultoría externa habrá devuelto el dinero que se le pagó desde el departamento de salud hoy nos llega el problema de araba de las juntas de araba de concejales y ayuntamientos de araba de sindicatos de araba de gasteiz de la llanada alavesa antes fue lekeitio zornotza

son plataformas de madres de ciudadanas de miles y miles de firmas solicitando pediatras en los centros de salud o en los servicios de urgencia tenemos dos parlamentarias que van a parir próximamente

estuve con un colectivo de pediatras de barrualde y me comentaron que en lekeitio por ejemplo una niña o un niño con un problema grave de salud

y ya el señor consejero me ha corregido y me ha dicho que hay urgencias veinticuatro horas de pediatría

cuanto mejor mejor por lo tanto parece que con urgencias de pediatría veinticuatro horas en el centro de gernika

que me comentaron los pediatras de barrualde de ir a cruces o a mendaro para un problema de urgencias graves desde la jubilación del pediatra de lekeitio parece que hay que modificarlo bueno no quiero ni pensar por ejemplo qué va a pasar este verano

sabeis por ejemplo que en lekeitio de nueve mil habitantes se pone en treinta y tres mil habitantes

de censo normal durante todo el año se invierte la pirámide de población habitualmente osakidetza siempre ha reforzado la pediatría de medicina de familia de lekeitio

esperemos que el servicio veinticuatro horas de urgencias en gernika

ni para navarra ni para cantabria ni para la rioja no hay pediatras en paro en el mercado laboral otros países funcionan de distinta manera

no tienen pediatras en la atención primaria tienen pediatras en los hospitales

es su cultura organizacional nosotros sí nosotros tenemos pediatras en los centros de salud o consultorios de ambulatorios desde la ley de bases de sanidad

seguro obligatorio de enfermedad del cuarenta y siete desde la creación del insalud de setenta y ocho y osakidetza nunca modificó

y generan comportamientos de uso por lo tanto nuestras madres y nuestros padres que notan que no tienen pediatras en sus centros de salud perciben

de sus derechos el tema de la ausencia de pediatras esto hay que resolverlo el problema no es solamente la cobertura es suficiente los médicos de familia funcionan bien está la población vasca perfectamente atendida

hay que escucharlas cuando escuchamos a las madres que son las que debemos oír

la asociación de pediatría de atención primaria del país vasco con el que hemos tenido el gusto de hablar

sin pediatras no hay buena atención a niños y niñas la sociedad de medicina familiar y comunitaria osatzen del país vasco con la que hemos tenido el gusto de reunirnos

dicen que atienden perfectamente a los niños y niñas de euskadi

la posición de elkarrekin podemos es que deben atender a nuestros niños y niñas quien esté cualificado para ello y quien tenga suficiente oficio como ser parlamentario no es ser buen político

hay que hacer un esfuerzo de incentivación de las plazas de pediatría de la atención primaria de escuchar y equilibrar los juicios de los distintos colectivos profesionales y sociales de escuchar sus propuestas y plantear algunas líneas de cambio sin duda otro modelo organizativo otro modelo de organización de la prestación

en vez de pediatras en la red tiene que explicarlo yo no estoy en contra pero tiene que explicarlo

como si fuesen normales tiene que hablar con las madres tiene que explicarlo en rontegi en zumaia en lekeitio en zornotza tiene que explicarlo no yo creo que los médicos de familia

nosotros pensamos que hay medidas más que de sobra para analizar el tema mantener la calidad y la cobertura de nuestro sistema sanitario y plantear el tema con criterios hay más variables

o sea que el ritmo de jubilaciones de pediatras en osakidetza se ha juntado con la natalidad

el partido popular y otros no estamos en contra están planteando incentivos demográficos incentivos para las familias porque euskadi está disminuyendo de población

se ha planteado varias veces el tema si se está planteando la incentivación de la natalidad hay que resolver el tema de la pediatría y de su cobertura

en números clausus de medicina de expedientes de medicina hay que revisarlos ahí están los jesuitas siempre al loro van a crear una facultad de medicina

lógicamente tenemos que hacer un buen diagnóstico de la situación y de la dinámica poblacional

de natalidad no porque araba tiene nueve coma ocho por mil habitantes pero salvatierra

por ejemplo cinco y seis de gasteiz duplican esa tasa las tasas de natalidad tiene comportamientos distintos en áreas geográficas distintas

tasas de natalidad porcentaje de cero a dos años los porcentajes de cero a dos años porque sabéis que los pediatras tienen un cupo de cero a catorce años y andan pidiendo hasta los dieciocho años pero a dónde vais hombre a dónde vais hasta los dieciocho años para qué cero a catorce años

diez veces más que de dos a catorce años luego el problema no es

el problema es qué porcentaje de cero a dos años tiene cada pediatra a efectos de trabajar de forma eficaz y eficiente necesitamos señor consejero

en el más corto tiempo posible vamos hablar de otros criterios

eskubide ukaezinak dira el gobierno vasco defiende a ultranza el derecho incuestionable de los niños y niñas a la salud

de calidad y sé que usted me cree si le digo que trabajamos día a día para defender los derechos de nuestros niños y niñas que en el caso de la salud usted sabe garantizados en euskadi periódicamente como usted ha dicho surge el debate de si tenemos suficientes pediatras para garantizar una atención sanitaria

que sacara usted este tema en el parlamento porque usted que conoce bien y de primera mano la atención pediátrica y los resultados en salud sabe

director de zona y comarca en la comarca barrualde sabe hay muchos más pediatras que los que había cuando usted dirigía la comarca y no estoy hablando ni de percepciones ni de sensibilidades

de nuestro país y de la oferta existencial y los resultados en salud de nuestro sistema sanitario mire yo soy como muchos de esta cámara nacido en la generación

en los años sesenta nacían en cruces más

y sin embargo el sistema tiene un treinta por ciento más de pediatras que lo que había en los años sesenta

que usted define no es que falten pediatras sino es cómo están distribuidos y no hay que mezclar la atención pediátrica con si hay un pediatra para sustituir al pediatra de ondarroa en el mes de agosto son cosas completamente distintas

periódicamente y con rigor la atención sanitaria de la población infantil con el objeto de mantener la calidad y la accesibilidad de las unidades de atención primaria y de los servicios de pediatría hospitalarios con sus correspondientes subespecialidades y también con las urgencias de pediatría

formado por pediatras de atención primaria pediatras hospitalarios tanto de hospitales universitarios como comarcales enfermeras pediátricas y técnicos del departamento de salud

analizando los recursos y resultado de los diferentes ámbitos de actuación para realizar propuestas de mejora

o sea que lo que usted me ha planteado se lleva trabajando desde la legislatura pasada eta egia esan gaur egun daukagun egoera

dezakegu como usted conoce y lo ha mencionado en el año dos mil once

ante el mismo debate el departamento en aquel momento osakidetza realizó un informe

no estaba un informe mapa sanitario del país vasco pediatría en atención primaria lo tiene usted a su disposición

de la población infantil sin embargo cabe destacar que la proyección demográfica prevista actualmente entre dos mil dieciséis y dos mil diecisiete prevé lo contrario prevé un descenso continuado de la población infantil

niños y niñas un trece por ciento además

el grupo de edad en el que está previsto el mayor descenso es el de cero a seis años que también como usted sabe es el que mayor número de visitas realiza a los servicios de pediatría la frecuentación de los menores de siete años es dos coma cinco veces mayor

y catorce años sin duda la proyección de nacimientos y los aspectos relativos a la distribución de edades de la población infantil debe tenerse muy en cuenta

medidas y alternativas de futuro bien

unos datos con la previsión actual de manera resumida

es la siguiente lamento contradecirle no hay cien plazas en atención primaria de cupos de pediatría cubiertas por médicos de familia no las hay a día de hoy

en atención primaria el ochenta y seis por ciento de la población infantil está atendida por cupos donde hay un pediatra

respecto a enfermería en el setenta y cuatro por ciento de las consultas de pediatría la enfermera se dedica

y exclusivamente a pediatría la media de cada cupo de pediatría es a día de hoy de ochocientos ochenta y nueve niños o niñas

por la asociación española de pediatría en cuanto a la accesibilidad un tema importante

todos los equipos de atención primaria en euskadi tienen oferta de pediatría cosa que si miramos hacia el norte miramos hacia francia

bélgica holanda dinamarca suecia podría seguir no ocurre y además en euskadi del total de equipos de atención primaria sesenta y ocho tienen también oferta de atención pediátrica con pediatra por la tarde

ha disminuido desde el año dos mil once aun así el año pasado muy importante los niños y niñas de euskadi acudieron a su pediatra de atención primaria seis coma uno veces de media

más de una vez cada dos meses sin contar las ocasiones en que fueron atendidos en urgencias y en las consultas de pediatría hospitalaria lo que claramente refleja que el modelo de atención es uno y el problema en salud es otro

disponemos de servicio de pediatría en diez de los doce hospitales de agudos con ciento ochenta y nueve pediatras disponemos de urgencias hospitalarias

y dato muy importante en relación con la formación de futuros pediatras en euskadi hay en este momento veinticuatro plazas acreditadas

lo que supone que actualmente hay hoy noventa pediatras en formación y en los próximos diez años saldrán

doscientos cuarenta nuevos pediatras en euskadi y por si no fuera suficiente el departamento ha solicitado la acreditación de tres plazas más que tenemos pendiente la respuesta por parte del ministerio y esperemos que sea

por último si analizamos la previsión de jubilaciones a la que usted también se ha referido le diré que en los próximos diez años alcanzarán los sesenta y cinco años ciento treinta y cuatro pediatras como ve una cifra bastante inferior a los pediatras actualmente

en definitiva estamos convencidos de que esto no es un problema de salud y además pensamos que en contra de lo que se estimaba en el año dos mil once la situación actual es notablemente

primaria están cubiertos por un pediatra el otro catorce por ciento están cubiertos por médicos de salud médicos de familia

y formación pediátrica entiendo que usted no me va a plantear que tenemos que tener profesionales con diez años de formación
y cuatro de mir en la bolsa de paro esperando a que coja vacaciones el pediatra de lekeitio eskerrik asko darpón jauna amaitu da zure denbora uria jauna zurea da hitza

solo faltaría y un hombre concienzudo con los problemas que tenemos claro que tenemos buenos indicadores de salud menos de cuatro por mil nacidos vivos de tasa de muerte infantil ochenta

de esperanza de vida al nacer etcétera etcétera el componente de la muerte infantil es fundamentalmente neonatal

yo no le planteo este problema los resultados de salud son excelentes en euskadi el sistema de salud tiene amplia cobertura yo le planteo un problema que bajo el punto de vista ciudadano porque usted es consejero y yo soy parlamentario y piense usted lo que piense y piense lo que yo piense hay

en distintos municipios hoy me llegan de juntas

me llegan del otro lado tenemos que dar respuestas a

que tiene la gente de nuestro sistema de salud no podemos permitir

sean sensaciones de pérdida cuando las cosas funcionan

entonces o explica claramente

atención de calidad excelente y la cobertura de las urgencias de pediatría de

y galdakao espero este verano que no tienen tienen cobertura suficiente para atender no ya el boom turístico de este verano o no ya la el supuesto aumento de natalidad que euskadi iba a tener gracias a las medidas de conciliación laboral

aquí necesariamente va a ver aumento natalidad y tenemos que tener todos los servicios sociales preparados el primero yo lo que le planteo es un tema mucho más sencillo y por cierto sería muy buena idea empezar bajo el punto de vista inclusive político la cobertura

el que insisto las urgencias pediátricas veinticuatro horas del hospital de galdakao del hospital de gernika bueno el hospital del centro de gernika y del centro

tengan veinticuatro horas todo el verano yo lo que le planteo

y podamos explicar los agentes sociales si yo no digo otra cosa y además saber por ejemplo que en álava

del conjunto de sus municipios es muy desigual salvatierra legutio

las tasas de natalidad promedios son el doble por ejemplo

por lo tanto sin duda usted lo ha mencionado bien hay un problema de distribución de recursos pero hay un problema de modelo de organización de nuestra red también hay un problema como usted

yo le propongo varios asuntos para abordar el tema sin tanta complacencia

es que merece la pena en osakidetza aprovechando que el pisuerga pasa por valladolid plantear otro modelo de organización

en donde se democraticen sus servicios tengamos relaciones con los colectivos ciudadanos

y podemos explicar que la enfermería debe controlar al niño sano no el pediatra

necesariamente otras franjas horarias donde centremos la atención pediátrica otros

y porcentajes de niños y niñas de cero a dos años aumentar el cupo mire no es suficiente lo que tenemos en bizkaia tenemos diez pediatras en

se ha llegado a trescientos cincuenta en numerus clausus quién tiene que hablar con la universidad otro modelo de relaciones laborales políticas explícitas donde los pediatras y las pediatras que salgan de nuestros hospitales bien formados vayan a los centros de salud

por razones geográficas y por razones de horario un plan director

está ya hecho sabemos que hay un equipo de expertos propios no consultorías externas que está trabajando el tema yo no tengo más que agradecimiento para esta iniciativa nos gustaría en este parlamento y en la comisión de salud en concreto conocer cuanto antes el plan director de pediatría

también a los sindicatos que a veces tanto molestan verdad pero otras
veces repiten verdades como puños esta es la situación eskerrik asko uria jauna bukatu zaizu denbora amaitu da zure

una corrección la escucha no es patrimonio de la izquierda la escucha

siquiera de la oposición en el gobierno escuchamos mucho créame lo que pasa es que claro nosotros tenemos la obligación de además de escuchar dar respuesta

efectiva mire si el problema

es que se mueve la población a las zonas costeras o al interior de la rioja para veranear y con las familias se mueven los niños bendito problema

pero nada más en euskadi gozamos de una asistencia pediátrica

usted sabe que no hay problemas importantes y conoce perfectamente el nivel de accesibilidad cobertura y especialización

estaré sumamente agradecido si lejos de generar alarma que no creo que la haya generado

que hay suficientes pediatras que hay más que en la mayor parte de los modelos sanitarios y que en los sitios donde no hay un pediatra hay un médico de familia con cuatro años de formación experiencia en pediatría

perfectamente atendida y que estamos convencidos de que en el futura en un futuro próximo habrá pediatras y que hemos avanzado mucho en la cobertura de la subespecialidades pediátricas en los hospitales en oncología pediátrica

en endocrinología pediátrica en alergología pediátrica en nefrología pediátrica

en muchos y diferentes puntos en unidades neonatales en unidades de cuidados intensivos pediátricos en hospitalización a domicilio pediátrica

y estamos trabajando para ofertar cuidados paliativos pediátricos a domicilio en todas las áreas del país vasco

compatibilizando con la primaria coincido con usted que uno de los aspectos importantes y mejor valorados por la población es la atención pediátrica

por la que el departamento mientras lo dirija yo va a continuar apostando y vamos a preservar trabajamos con los profesionales y con las sociedades científicas para que la organización sea adecuada y el número de profesionales suficiente

velamos también porque la atención pueda garantizarse en la lengua de elección sea euskera o castellano donde también tenemos problemas en algunos municipios en función del profesional asignado especialmente en la población pediátrica

de pediatría y su estabilidad laboral son las últimas ofertas públicas de empleo

la legislatura pasada pero reciente salieron sesenta y uno plazas de pediatría

en la ope del dos mil catorce dos mil quince se convocaron cincuenta y cinco plazas más

en total ciento cuarenta y seis plazas de pediatría

legislaturas por lo tanto señor uria le agradezco su interés le agradeceré más su colaboración en este problema donde creo que puede ayudar pero

la responsabilidad de la gestión del sistema sanitario de euskadi hemos aumentado la oferta y la accesibilidad a la atención pediátrica en términos generales

nos ofrece un panorama positivo estamos trabajando como usted bien ha recordado en un grupo de trabajo porque la opinión de los profesionales también nos preocupa

de formación hospitalaria tienen una gran tendencia a quedarse en los hospitales pero

podemos afirmar que la asistencia sanitaria pediátrica actual está garantizada que la calidad es buena

que la ejecutan tienen una formación adecuada y que así se va a mantener en el futuro eskerrik asko eskerrik asko sailburu jauna

espurgorako irizpideei buruz barrio jauna zurea da hitza muchas gracias presidenta buenos días a todos y a todas

buenos días también esta interpelación va enfocada

judicial forma parte también lo que se archive del patrimonio histórico documental y de los análisis de la documentación en este caso de la judicial

identificado un estudio en relación con las actas de las juntas de expurgo judicial o sea

institución aquella junta que prevé y decide la destrucción de documentos de

juzgados de euskadi vienen reuniéndose desde el dos mil seis en ese sentido se ha hecho un análisis de lo que se destruye de los documentos

audiencias asuntos penales juicios de faltas diligencias previas diligencias preparatorios sumarios asuntos civiles asuntos

su documentación ingente documentación por otra razón en el estudio de la documentación

correspondiente a dos iniciativas parlamentarias de la pasada legislatura en relación con las actas de

relativa a ese tema actas de expurgo judicial de la comunidad autónoma del país vasco pues lo cierto es que

complicados hay mucha información mucha documentación pues hemos detectado la necesidad de

objetivo la necesidad de diseñar o de elaborar o de aprobar

clave la destrucción en su caso de la documentación judicial la destrucción se lleva a cabo y ese documento ya no vuelve a existir a ningún efecto ni a un efecto

ni de información y en ese sentido pues nos ha preocupado un poco

esta afirmación desde luego se sustenta en

comprobar que documentos judiciales de una especial relevancia que afectan a actuaciones judiciales inacabadas o sin culminar han sido destruidos sin justificación y sin responder a criterios objetivos eso nos ha supuesto

de expertos una llamada de atención y

el marco normativo es el que es pero la necesidad de nuevos criterios y directrices y preocupados por alguna falta de esos criterios que preserven desde luego la documentación alguna de ellas sensible

efectivamente el gobierno vasco participa juntamente con la administración judicial el gobierno vasco

efectiva lo tiene que hacer porque de ahí parte la documentación que formará parte del patrimonio

o de los archivos provinciales en relación con la documentación judicial y en ese sentido esas juntas de expurgo

tienen que tener los informes los informes correspondientes del gobierno vasco y desde luego la presencia en esas juntas de expurgo bueno hemos visto que me parece que han sido once las reuniones

el representante del gobierno vasco pero ese no es el problema el problema es el trabajo efectivo

es la competencia del gobierno vasco la conservación del patrimonio documental en este caso los archivos históricos documentales hemos visto que ha habido documentos destruidos o sea que ha habido un determinado daño algunos documentos vuelvo a decir relevantes enseguida pondré algún ejemplo

de esa documentación que existe un problema quizá un poco de directrices de normativa mínima que

o de identificación de la relevancia de algunos temas

y ahí están las cuestiones legalmente sí le corresponde al gobierno vasco la salvaguarda y conservación del patrimonio documental judicial de euskadi está ahí

en las competencias que tiene independientemente de que confluya hay un trabajo conjunto de la comunidad autónoma en relación con esa conservación del patrimonio documental judicial de euskadi con la actuación de los juzgados y de los jueces que forman parte también

los informes y la presencia del gobierno vasco en relación con la preservación del patrimonio documental judicial

histórico está ahí está bien claro que a la hora de analizar

de documentación judicial sensible el gobierno vasco en su caso los responsables del gobierno vasco sí que tienen conocimiento y tenían conocimiento de ello y no faltan herramientas legales para ese patrimonio histórico documental yo quiero decir que se ha destruido por ejemplo el sumario del juzgado número tres de bilbao destruido en dos mil ocho del asesinato por eta en mil novecientos setenta y ocho de josé maría portell manso

maderal oleaga sumario del juzgado de instrucción número uno de bilbao destruido en dos mil ocho diego alfaro orihuela asesinado mil novecientos setenta y nueve sumario del juzgado de instrucción número cuatro de bilbao pedro

número tres de bilbao juzgado de instrucción luis maría uriarte alzaa asesinado en mil novecientos setenta y nueve diligencias previas del juzgado de instrucción número uno de durango manuel fuentes fontán asesinado en mil novecientos setenta y nueve

anastasio leal serradillo y los niños maría contreras gabarra y antonio contreras gabarra asesinados por la triple a en mil novecientos ochenta diligencias previas del juzgado de instrucción número uno de bilbao destruidos

hay más hay más no tan relevantes como este tipo de documentación y de sumarios pues estos han sido destruidos

de la investigación judicial quizá pero de la investigación científica del estudio del análisis histórico esos

con una relevancia histórica pues han sido destruidos bien no tenemos que hacer más que el análisis en este momento de esta situación esa situación se ha producido estos últimos años y

para que esta situación no se vuelva a producir o por lo menos el criterio sobre

la identificación de qué documentos se destruyen o de qué documentos se preservan

de un juzgado equis de una audiencia equis pues haya que preservar por su

jamás se tendrían que haber destruido efectivamente tenemos que

pero también tenemos que decir que seguramente podremos tomar medidas y entre todos hacer que situaciones de estas o que mejore el funcionamiento de la junta de expurgo los informes que los propios
patrimonio del gobierno vasco puedan hacer bueno en definitiva el señor consejero me responderá o valorará esta situación muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

legebiltzarkideok barrio jauna egun on guztioi señor barrio le agradezco la oportunidad que nos brinda para traer este tema al parlamento porque

y porque concita el interés del gobierno en el mismo desde la formación de este ejecutivo ha sido un asunto que ha atraído el interés y la preocupación tanto de nuestro departamento de cultura y política lingüística como del departamento de justicia

es un tema en el que los dos departamentos estamos trabajando conjuntamente y antes de entrarle permítame que ponga en contexto el origen de estas juntas de expurgo así como su composición y su funcionamiento el real decreto

de modernización de los archivos judiciales del dieciocho de julio reguló

estas juntas de expurgo de documentos judiciales la finalidad de las juntas es determinar los documentos judiciales que deben ser eliminados para transferir el resto a la administración competente en materia de patrimonio histórico el real decreto establece la composición de las juntas de expurgo adscritas al ministerio de justicia para que aquellas comunidades que tienen trasferida la competencia

y ese es el caso de la nuestra así confiere a la comunidad autónoma vasca la potestad de determinar su composición que en cualquier caso

tres vocales entre los que deberá haber un fiscal un técnico superior y un secretario judicial especialista en archivos

de la junta de expurgo la administración competente en materia de patrimonio histórico elaborará un informe de carácter vinculante

a cuyo fin podrá designar personal especializado para que acceda al archivo judicial en el que se encuentren por lo que se refiere a otras comunidades autónomas

han sido iniciativa de los departamentos correspondientes en materia de justicia en dos ocasiones en las de asturias y aragón han intervenido en esta decisión los departamentos de justicia y patrimonio histórico

vocales obligatorios señalados anteriormente se nombran técnicos especialistas en materia de archivo a propuesta de las instituciones competentes en materia de justicia y patrimonio histórico

de septiembre del dos mil cuatro de la viceconsejería de justicia del gobierno vasco y su composición quedó establecida de esta manera

un fiscal un técnico superior especialista en archivos designado por la administración competente en patrimonio histórico y un secretario judicial a los que se añade

dependiente de la dirección de relaciones con la administración de justicia y el representante del departamento competente en materia de cultura en este caso el jefe de archivos y

esta junta de expurgo se ha reunido una docena de veces desde su constitución el año dos mil cinco los criterios que han guiado la gestión documental de la junta durante todos estos años han sido los siguientes en primer lugar la conservación permanente para su trasferencia al archivo histórico de euskadi de la documentación comprendida entre

parte de esta documentación está descrita además en fichas sumarias

asimismo se han digitalizado otros ciento diez mil documentos de los cuales

son accesibles desde el portal web del sistema de archivos de euskadi el segundo criterio ha sido el de la conservación permanente

de jurisdicción civil quiebras suspensiones de pagos

expedientes de dominio adopciones y declaraciones de fallecimiento y en tercer lugar como tercer criterio

aleatoria de series de jurisdicción civil y penal entre dos mil seis y dos mil dieciséis se celebraron once reuniones de la junta de expurgo

de destrucción publicados en el boletín oficial del país vasco este es el contexto en el que se ha desarrollado la actuación

en cualquier caso y dicho esto sí le quiero señalar que este gobierno considera necesario realizar algunos cambios en la actuación y composición de esta junta han transcurrido más de doce años desde la creación de la misma y vista

pensamos que es necesario un modelo integral de gestión

para ello son necesarios cambios tanto en relación a la metodología como en relación a la propia composición de la junta y fruto de la detección de esta necesidad el departamento de cultura y política lingüística y el departamento de trabajo y justicia están trabajando en esta cuestión concretamente en las direcciones de patrimonio cultural y la dirección de administración de justicia como ya

requiere una reflexión profunda y un trabajo serio y concienzudo que nos permita subsanar los errores que efectivamente se han detectado en el funcionamiento de esta actividad de archivo y expurgo

gracias presidenta y brevemente también porque el señor consejero desde luego que ha tomado posesión hace poco en esta materia pero desde luego ha recogido un poco la necesidad

ya se ha identificado en relación con algunas cuestiones que tienen que ver con la protección

lo que ha dicho en relación con esa reflexión profunda en relación con esta cuestión

una moción de apoyo precisamente a esa profunda reflexión y a esa necesidad de algunos cambios

composición y el análisis y los informes que coinciden

de esa junta de expurgo es decir yo creo que esa es la cuestión ese es el planteamiento eso es lo que pretendíamos nosotros a la hora de identificar esa situación hemos hecho

fruto de hace poco hace más de un año de la identificación

actas y del análisis profundo y pormenorizado de las mismas donde se ha identificado esas circunstancias esas situaciones a las que yo he hecho

de instituciones que deciden destruir patrimonio documentos que algunos efectivamente se ha hecho mención a las testamentarias a las quiebras a muchas cuestiones civiles irrelevantes o que han pasado el tiempo efectivamente pero hay algunas cuestiones que efectivamente

más profundo más profesional más intenso en relación con lo que puede ser el trabajo posterior de informadores de científicos de

y delicadas en ese sentido yo creo que está ahí el país vasco tiene

consejero ha reconocido en relación con la gestión del patrimonio en relación con el patrimonio

una gestión de un patrimonio yo creo que importante y profesionalizada en relación con lo que tiene que ser el archivo el archivo histórico de euskadi pero también los tres archivos

documentación no solamente la judicial sino de otros muchos ámbitos administrativos o educativos o institucionales que tienen que ver con

al público desde luego buena parte de nuestra historia y buena parte de la historia de nuestras instituciones por eso mismo yo creo que teniendo teniendo los medios

teniendo los profesionales porque tenemos profesionales de primera en relación con la gestión de los archivos a los que supongo

se consultará para ver cómo se organiza

el análisis de la metodología y la composición de las juntas que tengan que decir sobre patrimonio documental en este caso judicial supongo que habrá otras muchas cuestiones que también afecten al patrimonio

es lo que habrá que apoyar y lo que habrá que decir esas directrices esas nuevas necesidades esos criterios ese caso se transformaran en normativa o se transformaran en decretos o en ordenes o en circular

pero que desde luego preserven el patrimonio documental que era lo que nosotros pretendíamos con nuestra iniciativa y que trataremos de trasladar en la moción correspondiente muchas gracias

de afinar esos criterios seguramente los criterios que en su día se establecieron y se usaron además de concitar un acuerdo general se pensó que eran los más idóneos de hecho se utilizó

en el ámbito del archivística que ha demostrado que en algunos casos

puede no ser el más adecuado sobre todo en aquellos casos en los que la destrucción de series

relevante por eso planteamos esa reforma que además debe incumbir no solamente a los expertos o a los técnicos en materia de patrimonio histórico creemos que es también importante el punto de vista del departamento de justicia y también

por eso bueno me ha anunciado la presentación de una moción pero bueno tengo interés en que tenga usted conocimiento de que al margen de las internas que hemos realizado en el gobierno hemos propuesto al juez decano de bilbao presidente de la junta de expurgo la creación de un grupo de trabajo

más concretamente queremos vincularlo también con la reforma judicial

porque creemos que todo ello además de redundar en una mejor conservación del patrimonio documental que tenemos podría ayudar también a la modernización de la gestión del sistema judicial vasco

deberían suspenderse los procesos de eliminación de la documentación hasta que no haya un acuerdo técnico amplio que ratifique la idoneidad de los actuales criterios de expurgo o sus sustitución

desde elkarrekin podemos presentamos hace dos meses una propuesta no de ley referida a la creación de una comisión interinstitucional que se ocupara de redactar un plan de viabilidad

un plan que tuviera como objeto diseñar un plan de ejecución que recuperara para la ciudadanía de gasteiz

para las creadoras y artistas la enmienda a la totalidad que presentaron pnv y pse contó con el apoyo del pp en la misma ustedes insistieron bastante en que fuera la caja vital

no lo veíamos necesario ni conveniente es la caja vital

una solución a un problema que ha creado la misma caja vital con fecha de cuatro de mayo

el señor jon urresti garcía una respuesta francamente sorprendente la verdad

no es operativo es decir que rechazan formalmente liderar esa comisión interinstitucional cuya creación apoyaron pnv pse y pp con cierta sorna por otra parte

un portazo en toda regla y una falta de respeto a la ciudadanía alavesa

qué iniciativa señor zupiria va a tomar el departamento de cultura al respecto del edificio krea una vez la fundación caja vital liderar la comisión interinstitucional cuya creación quedó aprobada en la propuesta no de ley

efectivamente como usted ha dicho en la comisión de cultura euskera y deporte del pasado cinco de abril se aprobó una proposición no de ley que decía lo que decía

a la fundación caja vital a que liderara una comisión con representación del ayuntamiento de vitoria la diputación foral de álava y el gobierno vasco así como representantes del mundo de la cultura alavesa y la mesa por la cultura mahaia para que estudiaran la viabilidad o no del proyecto krea

este parlamento ha recibido una respuesta del presidente de la fundación vital

a un compromiso adquirido por la vital en el año dos mil catorce y aún vigente hoy en día para acoger en el edificio un centro educativo de referencia sin perjuicio de que si no prosperara dicho proyecto se analicen otras alternativas

el proyecto krea no es compatible con la estrategia que orienta la obra social de la fundación vital y el uso al que quiere destinar el edificio de su propiedad en betoño por lo tanto solo puedo decirle que el gobierno vasco no puede más que ser respetuoso con quien ostenta la propiedad del edificio betoño y con quien debe tomar cualquier decisión sobre su uso

y a su patronato determinar el proyecto más adecuado para el edificio en cuestión y para su uso social confío en que la fundación vital propietaria

sobre sus posibles usos velará por los intereses de su obra social y de la sociedad alavesa a la que se debe eskerrik asko eskerrik asko

este miércoles la misma iniciativa ha sido debatida en las juntas generales de álava

que cuanta con los agentes culturales del territorio para reactivar krea ha sido aprobada por una mayoría como usted sabe en la cámara foral alavesa

y vamos a dejar que un proyecto como este se siga relegando por parte de la fundación vital que después de diez años y dieciocho millónes de euros invertidos

que el edificio se diseñó para un proyecto fallido por motivos económicos concretamente la merma importante de beneficios que obtenía kutxabank

del año pasado de dos mil dieciséis todos pudimos leer que

un doce por ciento más que el año anterior ahí lo dejo van a continuar las instituciones negando a los alaveses un espacio cultural multidisciplinar y participativo o se va a trabajar por la reapertura a corto plazo de krea

inspirado en el concepto de las fábricas de creación que es exactamente para lo que nació esto supondría también acabar con el desequilibrio territorial ya que en gipuzkoa y bizkaia tenemos ejemplos de espacios similares

de cada uno de estos territorios donde se ha demostrado que es imprescindible la implicación de todos los niveles institucionales

por qué ustedes insistieron tanto en que liderara la comisión la obra social de verdad les interesa que se reabra el espacio o es una coreografía

para no reabrir para darle un uso privado al espacio y que al final se beneficien los de siempre

a hacer una reflexión porque la apertura y funcionamiento de krea con gestión y carácter públicos y sin dar cabida a proyectos privados que no responden a las demandas del ecosistema cultural en araba es tan solo una cuestión

y está en manos de todas nosotras trabajar para que la cultura sea un derecho subjetivo de toda la ciudadanía así como defender espacios vivos que empleando modelos de autogestión igualitarios y desde la implicación y trabajo de muchas personas organizadas hacen

sean necesarios y hay que ayudarles y reconocer su labor de reconstrucción del barrio

y apaguen los sueños y proyectos de muchas personas gora errekaleor bizirik

para determinar cuál es el proyecto más adecuado y coherente con su obra social

debe ser respetuoso con la propiedad y con sus decisiones

el gobierno vasco estará dispuesto a analizar o a apoyar lo que pueda proponer la fundación vital pero solo en caso de que se produzca dicha petición

lo que se debe hacer con el edificio de betoño una comisión

la vital no ha solicitado y tampoco somos quien para imponer a la fundación un proyecto ni un uso determinado para su edificio el patronato de la fundación un órgano de representación social es el máximo órgano de gobierno y de representación de la fundación vital y su obligación es la de cumplir

con los fines que tiene establecidos como objeto social que es la obra social básicamente y administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación bancaria que no es un banco respetamos

más adecuado para su edificio en betoño y como le he dicho estaremos a disposición de la fundación para acompañarles en lo que sea posible en beneficio de toda la sociedad

kasazio helegiteari buruz barrio jauna zurea da hitza gracias presidenta también con el fin de conocer la
del gobierno vasco en relación con una sentencia vamos a volver a hablar en este parlamento lo hemos hecho de una manera bastante reiterada del edificio bellas artes de san sebastián y recordando además lo que hace pocos días salía también en los medios de comunicación en una

de san sebastián es un edificio centenario el cinematógrafo más antiguo de españa

que disponía desde el plan especial del área r de san sebastián de mil novecientos setenta y ocho trabajo de peña ganchegui moneo y bohigas la protección de elemento permanente al igual que la diputación al igual que el victoria eugenia o

muchas vicisitudes han pasado y todo esto acaba en relación con una sentencia

ya se habían dado pasos por parte del gobierno vasco por parte del departamento que usted ahora tiene antes su antecesora y los

mejor situación a la que se le había otorgado en relación con la protección pero la sentencia de la sala de lo contencioso administrativo del tribunal superior de justicia del país vasco estima subsidiariamente el recurso que interpuso

por el que se inscribe el edificio como bien cultural con categoría de monumento en el inventario general

esa sentencia dice bastantes cosas probablemente algunas de ellas discutibles y ese es el elemento fundamental porque la sentencia se puede recurrir ese es el elemento fundamental la sentencia dice que se puede interponer recurso de casación en un plazo de treinta días ante el tribunal

sala de lo contencioso administrativo del propio tribunal superior de justicia del país vasco está claro que se demuestra como procedente desde nuestro punto de vista y desde el análisis que hacemos

testado a la sociedad donostiarra en relación con esta protección

que siga incidiendo tal y como manifestó el gobierno vasco y sus órganos asesores la protección del edificio sí nos gustaría saber

qué va a hacer el gobierno vasco qué intención tiene en relación con la presentación del recurso de casación contra una sentencia para la que ustedes tienen argumentos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

del gobierno vasco y sus servicios jurídicos han analizado en profundidad la sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco metida en torno al asunto bellas artes

y ha decidido no presentar recurso de casación ante el tribunal supremo por lo tanto no vamos a dar continuidad al expediente de protección del edificio bellas artes la propia sentencia del tribunal superior de justicia reconoce

jurídica importante en torno a la situación de ruina o no del edificio

el tribunal superior de justicia dictamina y concluye que el edificio se encuentra en situación

esa decisión judicial modifica de manera sustancial la valoración

dicho expediente de protección consideró que el edificio no estaba en ruinas por qué porque lo hizo en base a los informes técnicos del ayuntamiento del san sebastián como recoge la propia sentencia al hilo de la jurisprudencia existente sobre la materia un bien de situación de ruina puede ser declarado bien cultural

que justifiquen el mantenimiento a ultranza del edificio en este sentido conviene recordar que según la orden de marzo del dos mil quince ya citada el edificio bellas artes se inscribió como un bien inventariado no como un bien calificado los calificados son aquellos bienes a los que se les reconoce su singular valor o su relevancia

no concurren valores suficientemente relevantes que justifiquen

por otro lado y ante la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el tribunal supremo debemos señalar que los servicios jurídicos del gobierno vasco desaconsejan esta opción por considerar muy poco probable una decisión diferente por parte de este tribunal

no se encuentra en situación de ruina y en esta nueva fase del procedimiento judicial no sería posible añadir o incorporar nueva documentación para demostrar otra cosa

es ahora competencia municipal determinar la declaración formal de ruina

es una mala noticia es una mala noticia efectivamente a la vista también de la sentencia que recoge pues las pretensiones

de la propiedad nosotros entendemos que hay margen de debate y hay margen de análisis de esta cuestión sobre todo viendo en qué estaba fundamentada las decisiones del gobierno vasco a la hora de la protección del edificio es una mala noticia yo

ya no hay tiempo para una iniciativa de urgencia para una moción en este caso o para una proposición no de ley aunque fuese de urgencia no hay ningún tiempo estaba bien claro que los días

que tiene hacer una reflexión una última reflexión en relación con la cuestión

hay elementos muy discutibles no tenemos tiempo en la propia sentencia elementos que sí que tienen valor y factor jurídico que poner sobre la mesa pero bueno en cualquier caso llegado a este momento si nosotros le décimos o le pedimos que recurra y usted

lo que sí se tiene que poner de acuerdo ya definitivamente con el ayuntamiento de san sebastián

un edificio como el bellas artes que ha sido emblemático que es emblemático que es historia de san sebastián y de euskadi

barrio jauna yo voy a insistir la decisión entorno al futuro del edificio bellas artes está ahora en manos del ayuntamiento de san sebastián y

por testimonio directo suyo sé que su intención es la de apostar por un uso que convine el uso público del edificio y su protección

y se trata de una cuestión que ahora mismo está tratando el ayuntamiento de san sebastián y que va a tratar con la propiedad de la que en todo esto se ha hablado muy poco pero que creo que tiene también mucho que decir la decisión de inscribir el bellas artes como un bien inventariado fue en su momento la decisión

la posición que ahora adoptamos de no dar continuidad al expediente del edificio desde un punto de vista técnico según nuestros juristas

eguerdion guztioi señora consejera la ley de policía del país vasco tiene ya veinticinco años

distintas modificaciones creo que tanto usted como este grupo considera necesaria una nueva modificación

en determinados aspectos y la modificación de la ley ha sido postergada en varias ocasiones en la legislatura del gobierno del partido socialista de euskadi del lehendakari patxi lópez se presentó una modificación y se tramitó

las enmiendas y a pesar de que este grupo ofreció retirar sus enmiendas con el fin de que la ley se modificase porque se veía necesaria se adelantaron las elecciones la legislatura concluyó y la modificación decayó en la pasada legislatura el consejo de gobierno aprobó el proyecto

remitiéndose en mayo a esta cámara se aprobaba casi un año después de la fecha que estaba prevista en el calendario legislativo

evidentemente cuando se presentó ya se sabía que no daba tiempo a su tramitación porque una ley tan importante como esta requiere comparecencias enmiendas debates que llevan un tiempo y que no puede hacerse a la carrera

tiene la tentación también de decirlo se apeló entonces a la voluntad de los grupos en esta cámara para que se aprobase antes de que se finalizase la legislatura y se nos quiso responsabilizar de que finalmente esta ley no se aprobase esta acusación no tenía ningún fundamento por lo tanto el hecho cierto fue que pasó la legislatura anterior sin que dicha modificación tampoco se produjera esta legislatura el calendario legislativo se aprueba el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete y en dicho calendario la presentación

para casi finales del año que viene del dos mil dieciocho tal y como he dicho antes y como recoge la exposición de motivos del proyecto de ley que se presentó en la pasada legislatura correspondiente a la quinta modificación de la ley de policías es decir de la ley cuatro barra mil novecientos noventa y dos esta ha sido modificada en diversas ocasiones

parece que nunca es mal momento para hacerlo verdad señora consejera además de esto digo

reforzando legalmente las modificaciones de dicho modelo se planteaba una comisión de buenas prácticas y reforzar el sistema de quejas ekinbide se introducían novedades en lo relativo a la selección e ingreso en la ertzaintza y también en lo relativo a la promoción interna carrera

la del superintendente asimismo se daba una nueva regulación a la situación administrativa de segunda actividad

de que al menos un treinta y tres por ciento de mujeres estén presentes en la misma

disciplinario y se preveían también prescripciones que afectaban a la policía local reglamentándose la figura del alguacil por cierto largamente reclamada por los propios alguaciles el que exista una regulación legal con respecto a ellos

señora consejera si todos estos nuevos aspectos van a estar regulados en el nuevo proyecto si se van a mantener o no si el proyecto de ley va a ser el mismo prácticamente o se van a introducir nuevos cambios

en el caso de que no se vayan a modificar aspectos en el caso de que ese proyecto de ley que se presentó en ese momento siga vigente quisiéramos preguntarle por qué tras tomar posesión el nuevo gobierno no se inicia de inmediato el iter no se inicia de inmediato el camino dado que el trabajo estaba muy avanzado

o haberse vuelto a aprobar el proyecto pero al pedir informes evidentemente la redacción de los mismos hubiera sido muchísimo más rápida porque estaban ya realizados

el texto sería el mismo por qué entonces se plantea que no pueda presentarse en este cámara hasta finales del dos mil dieciocho pudiera ser

porque algunos aspectos del mismo es verdad que tenían contestación quisiéramos preguntarle por tanto si la protesta de algunos sindicatos sobre algunos aspectos de dicho proyecto este se piensa modificar porque es bueno que la modificación de la ley participen

es bueno por ello tener en cuenta la aportación de los ciudadanos evidentemente pero también de los agentes de los no sindicados y de los que lo están cuando presentó el borrador de proyecto por ponerle un ejemplo

censuraron aspectos de la ley como por ejemplo el relativo a la comisión de control considerándola una comisión política y contraria a nuestra legislación es más en sus palabras la consideraban una aberración

pero fue sustituida por una comisión de buenas prácticas que habría que saber

en el proyecto también se decía como le he dicho antes que se venía a confirmar el modelo de organización interna que lo sustenta y con relación a la organización interna del mismo la verdad es que según la consejería en algunas interpelaciones que esta

no ha traído ninguna disfunción no ha producido ningún problema

y por lo tanto no hay que cambiar absolutamente nada y no se planteaba

cambiar absolutamente nada sin embargo la realidad no es tan idílica como nos la ha planteado muchas veces la señora consejera la organización interna ha tenido mucha contestación mucha y la sigue teniendo

esa organización es perfecta no se corresponde con la realidad que es manifiestamente mejorable y que si la modificación de la ley no debiera de servir para refrendar esa organización sino precisamente para todo los contrario para modificarla por eso señora consejera desde nuestro grupo

hacerle una serie de cuestiones le parece importante la modificación de la ley de policía sí o no si le parece importante

la razón de este retraso es que se van a producir modificaciones y sí nos gustaría que nos adelantase en ese caso qué modificaciones se van a producir qué parte del anterior proyecto ahora ya no se va a incluir o no va a estar vigente qué parte que no aparecía en ese proyecto ahora se va a incluir son las modificaciones tan profundas que justifican ese retraso

no podrían haberse introducido en la ley en el proceso de tramitación de la ley mediante enmiendas de los grupos

no cree que pudiera adelantarse la presentación del proyecto porque para algunos miembros

el inicio de ese proceso de la quinta modificación de la ley de policía es importante y así lo están demandando esperamos su respuesta eskerrik asko

onarpenerako egutegian ere aurreikusia dago como le decía señora llanos

ocasión con relación a este anteproyecto de ley

vasca ha de ser una aportación positiva para el desarrollo del modelo policial que queremos para euskadi una policía integral en conexión

vasca una sociedad cambiante también en las cuestiones que se refieren a la materia de la seguridad una policía plenamente integrada en los estándares de seguridad europeos y en sus órganos de decisión y de coordinación

como bien sabe usted hemos venido reclamando insistentemente y que recientemente gracias al acuerdo entre su partido el partido popular y el partido nacionalista vasco ha sido objeto de medidas concretas de medidas positivas una policía que ajustada a la realidad delincuencial de cada momento desarrolle políticas

que se nos pueden ir presentando lo que el anteproyecto de ley ha de perseguir es una nueva modificación de la ley existente para implementar una serie de avances y mejoras que nos permitan seguir disponiendo de unos servicios policiales eficaces

adecuadamente a la gestión integral del plan general de seguridad pública de euskadi se trata por tanto de seguir disponiendo de los servicios policiales que mejor

a la consolidación de la convivencia democrática al bienestar general de toda nuestra ciudadanía y a la seguridad de nuestros mecanismos también de

en el consejo de gobierno se aprobaba el proyecto de ley que llegó a este parlamento para su debate y aprobación y es cierto también que no se produjo ningún movimiento en el parlamento usted me trasladó sus reproches

de esta ley y también en ese momento tuve ocasión de oírle

más sindical pero lo cierto es que no se hizo ningún movimiento para que

decayó y por tanto se ha de reiniciar el camino de una nueva legislatura para que vuelva a este tablero al tablero del juego

aprobada esta ley como bien sabe usted forma parte del programa de gobierno y está incluido en el calendario legislativo con la fecha prevista para su aprobación en el segundo cuatrimestre del dos mil dieciocho ha de entender usted también que aquí el texto que recogía la voluntad

de un gobierno monocolor pues ahora

la voluntad de un gobierno de coalición gobierno formado por el pnv y el partido socialista de euskadi

que debe contar y contará con más probabilidades de partir con un consenso más amplio

ha de tener el apoyo parlamentario del partido nacionalista vasco y del partido socialista

nuestra intención es aprobarlo como le decía en consejo de gobierno

evidentemente también somos conscientes de que para su aprobación hay que concitar

el interés que ha mostrado usted por esta ley una ley importante por cuanto regula una de las primeras instituciones

y por tanto también nuestro interés en que esa tramitación se acelere lo más posible

estamos en ello estamos trabajando y nos esmeraremos para que esos plazos sean

los mínimos precisos una vez que remitamos este proyecto de ley al parlamento

de presentar sus propuestas de debatirlas de mejorar ese proyecto de ley sin duda con sus propuestas y con los acuerdos que se adopten tendrán ocasión por tanto de plantear cuanto consideren necesario

plantear para que sea debatido y aprobado de cualquier manera seguimos considerando que el texto que se presentó en la pasada legislatura

y quiero recordarle que en todo el proceso de tramitación la legislatura pasada ya ese anteproyecto contó con numerosas aportaciones y alegaciones tanto por parte de los

comisiones obreras ugt ela también con aportación de la

con aportaciones de la asociación de jefes de policía local de euskadi en fin es un texto de ley con el que partíamos que efectivamente adapta la ley de policía vasca del noventa y dos como recordaba usted y sus posteriores modificaciones a las necesidades actuales

la ley al modelo policial que queremos al modelo de policía vasca que necesita euskadi modelo policial que tiene que estar en permanente

en cualquier caso insisto procuraremos en todo momento acelerar esos trámites lo más posible pero sea usted consciente también que merece alcanzar ese también consenso dentro del propio gobierno

posterior tramitación parlamentaria debería evitar

que no nos lleven a un eterno retorno como suele pasar en ocasiones entendiendo la importancia que todos los grupos parlamentarios ustedes especialmente les confieren a este proyecto de ley

sobre todo para la organización como es la carrera profesional un planteamiento de carrera profesional

que permite entre otras cosas acceder a los distintos grados de desarrollo profesional que están previstos

puesto de trabajo regulaba las

para tareas que requieran de conocimientos específicos y establecía como usted bien ha recordado o establece ese texto

medidas para la incorporación de más mujeres a la ertzaintza mañana precisamente

y afortunadamente el número de mujeres que han solicitado presentarse a esas pruebas también ha crecido estamos hablando de un veintisiete por ciento entre otras cosas efectivamente a todo eso

la nueva ley en ese sentido confío que llegado el momento el momento de su tramitación también se genere un debate enriquecedor insisto con contribuciones que agilicen su aprobación para contar en el mínimo tiempo posible como es nuestro deseo y como es nuestro interés con una nueva ley de policía vasca un marco legal que facilite el desarrollo actual de la

un marco legal que permita configurar y coordinar mejor los servicios

desarrollo e insisto agradezco ese interés que ha mostrado por esta ley y su interés por agilizar la tramitación

lo antes posible y entiendo que ustedes pondrán todo su interés para que esa tramitación parlamentaria

gracias de nuevo señora presidenta señora consejera si yo estoy de acuerdo claro que estaba previsto en el anterior calendario legislativo está previsto en este está recogido en el programa de gobierno está recogida en la agenda lo que pasa es que también estaba recogida en la anterior legislatura de lo que se trata es que pase

ese paso de estar en los documentos a ser una realidad se hizo un año más tarde de lo que estaba previsto

en consejo de gobierno en el segundo cuatrimestre del dos mil dieciocho como se retrase un año como se retrasó en la anterior legislatura volvemos a las mismas volvemos a la presentación pues casi al final y entonces

ya se lo digo en la tramitación de la ley pero es verdad que lo que no se puede es aducir que es que la aprobación del proyecto de ley

puedo estar de acuerdo y que por lo tanto eso se tiene que cumplir y luego se quiere pisar el acelerador en lo que es importante y probablemente más importante

tiene la competencia de aprobar esa ley es este parlamento luego el debate en este parlamento que es el que tiene la competencia para aprobar esa ley tiene que ser importante y no tenemos que estar pisando el acelerador

innecesarias pero desde luego sí con el debate y las

que fueran necesarias y yo también puedo estar de acuerdo en que antes ustedes tenían un gobierno monocolor de un solo partido y ahora

partidos políticos no me puedo creer que se tarde hasta el segundo cuatrimestre del dos mil dieciocho el debate con el grupo socialista o con el partido socialista para ver el proyecto de ley las modificaciones que hay que introducir en el proyecto de ley de policía no me puedo creer que se tarde tanto no me puedo creer que se tarde tanto bueno es verdad que luego están ahí todos los informes pero no creo que las modificaciones iban a ser tan

en cualquier caso hay distintas técnicas legislativas que es se presenta el proyecto como estaba

así porque además durante la tramitación de la ley es verdad que probablemente tenga más consenso que la ley anterior pero también necesitan otro partido político para sacar la ley

no suman suficientes votos para que ellos mismos salga tal cual se presente en este parlamento y nosotros desde aquí le décimos que mostramos nuestra voluntad

para conseguir acordar esa ley pero también les digo que es verdad que ustedes han cogido y me consta que han recogido aportaciones de quienes

es cierto que otras aportaciones no las han recogido y que probablemente pues algunas de ellas sean aportadas vía enmienda como por ejemplo

profesional también le reconozco la importancia de la ley aunque con algunas de las cuestiones probablemente no estemos de acuerdo como por ejemplo el tema de la edad de acceso

porque da muchísima más seguridad jurídica que no regulado vía reglamentaria con lo cual es importante que ese aspecto

nosotros discrepemos con la regulación concreta que la ley establece y luego ya por último y no voy a aprovechar como

para introducir las críticas a la organización

esas críticas a cómo está la organización en este momento la organización policial no son unas críticas sindicales como usted ha dicho yo no las traigo aquí

la organización y que ya le digo que hoy no me voy a referir a ellas pero que muchas las puedo mantener perfectamente porque persisten porque influyen en el buen funcionamiento de la policía
y como usted dice de un modelo policial adaptado a las necesidades que en este momento tienen los vascos eskerrik asko llanos andrea beltrán de heredia andrea zurea da hitza

a reiterar lo que ya le he expresado antes ya sé que en cuanto a la apreciación sobre la idoneidad de los plazos establecidos seguramente no nos vamos a poner de acuerdo pero también hay que ser realistas podemos seguir eternamente en el

hay un compromiso adquirido por este gobierno de traer la ley de aprobar

insisto le agradezco esa preocupación que ha mostrado por el tiempo que nos pueda llevar su aprobación y por el tiempo que nos pueda llevar la tramitación

cuestiones que llevan su tiempo pero lo sustancial

buscar y trabajar los consensos necesarios que posibiliten la aprobación definitiva y eso lo vamos a hacer

establecidos porque seguimos considerando que el proyecto de ley presentado aquí en la legislatura pasada el texto de ese proyecto de ley es un buen

de ley un anteproyecto en su momento que modificaba y adapta la ley de policía vasca al modelo de policía que

que mejor responde a las necesidades de euskadi un modelo de policía cercano comprometido con la sociedad en la que se integran los agentes por cierto los agentes que están en prácticas ahora la veinticinco que se integrarán en ese modelo policial inmediatamente

participarán también esas personas que serán seleccionadas a partir de ese examen que se iniciará mañana

de policía al que pertenecerán esos más de

locales también y las incorporaciones que a futuro se puedan realizar y que se puedan efectuar pero creo que le insisto con ese interés

los plazos y agilizar al máximo los trámites también hay que ser

la previsión establecida para el segundo cuatrimestre de dos mil dieciocho considero como ha dicho usted también la necesidad de alcanzar acuerdos sabemos y somos conscientes de que con dos partidos políticos no es suficiente pero lógicamente

hay un mayor número de votos

y confío además que en esa tramitación parlamentaria podemos debatir recoger aportaciones

aquí creo que es importante integrar el contenido del código europeo de ética de policía que planteábamos en ese texto y creo que es importante también

en lo que planteábamos en la dación de cuentas tanto de cara a la propia organización como de cara a la sociedad decía usted y efectivamente y seguimos apostando por esa comisión de buenas prácticas de la policía del país vasco con carácter

y seguir trabajando desde la academia también para unificar los procedimientos por ejemplo de selección de policías locales algo que por cierto ya está

es importante desde nuestro punto de vista impulsar esas medidas de acción positiva que posibilite también una mayor presencia de mujeres en la ertzaintza y no solamente ahí sino que posibilite también un mayor ascenso

buscar las vías para que el ascenso dentro de la propia organización de las mujeres tenga mayores posibilidades

en definitiva son muchos los aspectos que hay que recoger y que hacen necesaria coincido con usted la modificación de esta ley de policía vasca pero insisto el compromiso del gobierno de gobierno de coalición el compromiso adquirido al aprobar el calendario

esta ley pueda ser aprobada dentro del segundo cuatrimestre de dos mil dieciocho pero insisto estamos trabajando para que

ley de policía adaptada y acorde con las necesidades actuales de la organización y también las necesidades y las demandas de la sociedad vasca eskerrik asko